beraz epea ere bete egin da el presente decreto legislativo se ha elaborado en cumplimiento de la habilitación conferida en la disposición final cuarta párrafo tres de la ley dos barra dos mil diecisiete

de la comunidad autónoma de euskadi para el año dos mil diecisiete

a los seis meses desde la entrada en vigor de dicha ley refundiera en un solo texto la ley catorce barra noventa y cuatro de treinta de junio de control económico y contabilidad de la comunidad autónoma de euskadi y las modificaciones introducidas

leyes posteriores asimismo de conformidad con el artículo cincuenta y dos punto cuatro de la ley siete barra ochenta y uno de treinta de julio de gobierno dicha autorización

aclarar y armonizar los textos legales que hubieran de ser refundidos así como la de sistematizar y realizar las adaptaciones terminológicas que fueran necesarias

vasco dentro del plazo establecido ezer esan aurretik

hau da herri kontuen epaitegiari dagokion kontrolarekiko antes de nada cabe recordar que la ley catorce barra noventa y cuatro de treinta de junio de control económico y contabilidad de la comunidad autónoma

supuso un nuevo paso hacia la progresiva configuración de la hacienda pública de euskadi y la modernización de las estructuras administrativas de la comunidad autónoma al incorporar

con carácter estructural y completo del control económico interno de la administración pública de la comunidad autónoma de euskadi distinguiendo este control económico del control del carácter externo que ejerce el tribunal vasco de cuentas públicas de acuerdo con su normativa específica como saben de sobra el control de carácter económico interno se ejerce respecto a la actividad económica de los sujetos y entidades de la administración de la comunidad autónoma a los que la propia norma se refiere conforme a la misma

del control contable y el control interventor en sus distintas modalidades

el control económico fiscal el control económico normativo que comprende el control organizativo y el control económico administrativo el marco regulatorio de la ley catorce barra noventa y cuatro de treinta de junio se completó reglamentariamente mediante el decreto cuatrocientos sesenta y cuatro barra noventa y cinco de treinta y uno de octubre por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la administración pública de la comunidad autónoma de euskadi no obstante

de la comunidad autónoma de euskadi ha experimentado diversas modificaciones de distinto alcance e intensidad operadas por las siguientes disposiciones legales según el orden cronológico de las mismas la ley siete barra noventa y siete

por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se modifica la ley de principios ordenadores de la hacienda general

el decreto legislativo uno barra noventa y siete de once de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la ley de principios ordenadores de la hacienda general del país vasco nueve barra dos mil cuatro de veinticuatro de noviembre de la comisión jurídica de euskadi la ley cinco barra dos mil seis de siete de noviembre de patrimonio de euskadi a su vez derogada por el decreto legislativo dos barra dos mil siete de seis de noviembre de aprobación de texto refundido de la ley de patrimonio de euskadi

de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil doce

le ley seis barra dos mil dos de uno de marzo por la que se modifica

la ley de control económico y la contabilidad de la comunidad autónoma de euskadi

para la regulación de las entidades participadas o financiadas mayoritariamente por el sector público de la comunidad autónoma de euskadi y por último

los presupuestos generales de euskadi para el año dos mil catorce

una cierta dispersión del texto que integra la regulación vigente en materia de control económico y contabilidad de la comunidad autónoma de euskadi dispersión que justifica la presente iniciativa en cualquier caso la refundición llevada a cabo ha respondido al mandato parlamentario limitándose en general ha recoger en un texto único

anteriormente señaladas consolidando las modificaciones legales operadas desde la aprobación inicial de la ley

la ordenación de los artículos de la ley original aunque reasigna su numeración como consecuencia de las modificaciones operadas y en particular en las disposiciones

del texto también se ha aprovechado para sustituir las menciones concretas de departamentos u órganos por las referencias a las correspondientes áreas de actuación

así como para efectuar las adaptaciones necesarias para evitar el uso sexista del lenguaje se han sustituido las referencias a la administración pública o a la administración general e institucional por su ampliación al ámbito del sector público de la comunidad autónoma de euskadi y las entidades que la integran se ha actualizado la redacción

conservando la estructura original pero suprimiendo las referencias a normas o cuestiones que han quedado superadas con el paso del tiempo en conclusión la elaboración del texto refundido no se ha reducido a la mera reformación de un texto único sino que se han aprovechado las posibilidades que ofrece la delegación para regularizar aclarar y armonizar así como para realizar las adaptaciones necesarias todo ello ajustándose a los límites del ejercicio de la legislación delegada tal y como han puesto de manifiesto

y obrantes en el expediente remitido a este parlamento el texto refundido contiene veintinueve artículos agrupados en tres títulos además de dos disposiciones adicionales y uno disposición final manteniendo la estructura

vigente hasta ahora y conlleva la derogación de esta norma así

que se opongan a lo establecido en el mismo el nuevo texto refundido no comporta alteración sustantiva para la estructura organizativa de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco

ni tampoco implica coste económico careciendo por tanto de incidencia presupuestaria en definitiva y

la seguridad jurídica en el campo del control económico interno y por muy técnica que parezca tiene una importancia capital a la hora de facilitar su aplicabilidad de los hechos económicos que surgen en la hacienda general del país vasco cada ejercicio azkenez eta amaitzeko uste dut arlo ekonomikoaren inguruan

erraztuko da testu bateratu honekin por ello creo firmemente que la aprobación

que hoy le solicito viene a renovar la confianza que el gobierno tiene en la eficacia de este autocontrol económico que ejerce sobre sí mismo el propio ejecutivo

es una de las mejores garantías para su correcto funcionamiento

muchas gracias señora presidenta muy brevemente porque como nos ha explicado el señor consejero ya estaba prevista en la ley de presupuestos traer este texto refundido

recogidas en un texto son más comprensibles para los ciudadanos incluso para nosotros que somos al final los que

que manejar y trabajar pero sí le pediría al señor consejero y al resto del gobierno cuando traigan un texto refundido como este que en la disposición derogatoria

aparezcan claramente definidos qué otros artículos de otras leyes

nos encontramos también muchas veces con el mismo problema se hace referencia el señor consejero ha citado varias leyes incluso algunas

del texto refundido que quedan afectadas por esta ley y sí sería conveniente en la disposición derogatoria de los textos refundidos que quede claramente
qué otros textos quedan derogados a parte del genérico que sustituye inicialmente nada más y muchas gracias eskerrik asko

egun on buenos días el grupo socialista ha votado a favor del texto refundido de la ley de control económico y contabilidad del país vasco basándonos en las siguientes consideraciones hace seis meses los socialistas vascos en el mes de abril votamos también favorablemente la ley dos barra dos mil diecisiete de once de abril de presupuestos generales

al gobierno para refundir en un solo texto de la ley catorce barra mil novecientos noventa y cuatro de treinta de junio de control económico y contabilidad de la comunidad autónoma de euskadi las modificaciones introducidas en la misma por otras leyes posteriores esa autorización

aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos así como la de sistematizar y realizar las adaptaciones terminológicas que fueran necesarias en segundo lugar este decreto legislativo consolida las modificaciones legales operadas desde la aprobación inicial de la ley de control económico y contabilidad sustituye las menciones concretas de departamentos y órganos por la referencia a las correspondientes áreas de actuación

y efectúa además diversas modificaciones terminológicas el cambio más relevante

de la comunidad autónoma de euskadi allá donde originariamente se aludía a la administración pública o se hacían otras menciones en tercer lugar

ninguna alteración sustantiva para la estructura organizativa de la administración general ni para sus organismos autónomos ni entidades encuadradas en el sector público y la afección en las materias propias de la hacienda general del país vasco y cómo son identificadas

de la hacienda general del país vasco es inexistente

se concibe como un control que trata de ser integral y poner el acento más

que en normas y controles posteriores sobre la actividad económica que pueden modificar los modos de actuar económicos los rasgos del control económico que se pretende con el texto refundido

así como también el dinámico en quinto lugar se pretende también modernizar las estructuras administrativas de comunidad autónoma

que ha de proporcionar menores tasas de burocratización y mayor agilidad en los órganos llamados a gestionar y controlar el sector público desde su vertiente económica hemos votado a favor en sexto lugar porque este decreto legislativo tiene además

de la asesoría jurídica y cuenta también con el informe de la oficina de control económico en relación con este proyecto que también es favorable se comprende así la justificación de la iniciativa en la dispersión del texto que integra la regularización vigente en materia de control económico y contabilidad

por todas estas razones hemos dado nuestro voto favorable al decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de control económico y contabilidad de euskadi muchas gracias

erreala eta zinezkoa den berdintasuna nahi dugu queremos una euskadi para el cien por ciento de su población para todas las mujeres y para todos los hombres que día a día habitan

una sociedad mejor y una sociedad de iguales estamos plenamente convencidos de que tenemos una necesidad imperante de avanzar hacia una mayor igualdad

que no incorporen la perspectiva de género ni acciones positivas son políticas excluyentes

y reproducen así las desigualdades que generan discriminación y violencias machistas para que la igualdad sea real y para que la igualdad sea efectiva en todos los ámbitos de la vida es imprescindible que todos y cada uno de

en el marco de sus competencias se hagan responsables y comprometan recursos medidas y acciones concretas y hoy nos hemos abstenido sí nos hemos abstenido porque queremos manifestar nuestro absoluto desacuerdo a la medida reiterada de incluir medidas para impulsar la igualdad en el ámbito económico la industria y la tecnología el jueves pasado

votaron en contra de incorporar la igualdad en el clúster de la formación universitaria en ingeniería ciencia y tecnología de euskadi les parece esto serio

se aprueba este decreto sin contar con un informe de evaluación previa

ni tampoco un informe que justifique por qué no se debería realizar sabemos que en dos mil doce hubo un acuerdo de consejo de gobierno que establece

quedan excluidos de la obligatoriedad de realizar una evaluación previa pero no quieren ustedes ser pioneros entre la igualdad entre hombres y mujeres pues demuéstrenlo demuéstrenlo ante esto

y recortar responsabilidades de los departamentos a la hora de asegurar que todas las políticas públicas contribuyan a la igualdad y la economía creemos también que es clave para la igualdad

en el desarrollo económico de euskadi mientras las acciones que toma este gobierno muchas veces

y por eso precisamente nos hemos abstenido porque creíamos que era necesario que hubiera un informe en función del impacto de género mila esker

el grupo socialista propone hoy a esta cámara que demos un paso más en la clarificación de toda la gestión pública una ley del sector público que pretende

administraciones para ganar en eficiencia con mecanismos de evaluación y de racionalización de todo el entramado público para evitar duplicidades

es un paso más que se suma a la ley de incompatibilidades que acordamos ya en la pasada legislatura y a la ley de transparencia que ya se ha puesto en trámite tres patas de una misma idea que los socialistas empezamos a intentar ordenar hace dos legislaturas y que esperamos que culminen con las aportaciones de todos los grupos durante

en el segundo cuatrimestre del año dos mil dieciocho tanto los socialistas como nacionalistas hemos visto la oportunidad de que partiendo del texto presentado en la anterior legislatura

anticipar esta previsión con esta iniciativa y las proposiciones ya registradas por esta misma vía de las leyes de formación profesional

el grupo socialista junto con el grupo nacionalista colaboramos en agilizar el ritmo legislativo de esta cámara la intención que tenemos los socialistas con esta proposición de ley es convertirla en una ley de cabecera que organice el conjunto de normas que estructuran el sector público vasco

disfunciones y contradicciones que genera actualmente la amplia legislación vigente sobre la materia pero no se trata tan solo de codificar la regulación existente

la proposición de ley tiene una ambición mucho mayor y es que quiere aportar coherencia sobre la organización y el funcionamiento del entramado público de nuestra comunidad

y el funcionamiento de los tres niveles institucionales de euskadi la ley tiene como objetivos principales desde nuestro punto de vista la simplificación y la eficacia y así el texto a través de sus cinco títulos regula de forma ordenada y cohesionada el sector público vasco

este como el conjunto de administraciones públicas organismos autónomos entes públicos de derecho público o de derecho privado sociedades públicas y demás entes instrumentales

los que los distintos niveles de gobierno tanto el autonómico el foral o el local de la comunidad autónoma se sirven para el ejecución de las políticas públicas en defensa del interés general

se regula su funcionamiento y sus obligaciones se delimitan las competencias de cada entidad pública se establece la obligación de colaboración y coordinación entre administraciones

sus principios los principios de esta ley afectarán a todos los niveles institucionales sin perjuicio del correspondiente ámbito competencial de cada una de ellas

y de participación de la misma la administración electrónica y se pone el acento en procesos de evaluación de la gestión

así en este sentido se establece la exigencia para que se elabore un informe en el plazo de un año

su integración administrativa su dependencia y sus funciones

que ha de concluir con una propuesta de simplificación de la estructura existente

se amplían las funciones del consejo vasco de políticas públicas locales que se creó por la ley municipal para el estudio y elaboración de propuestas con relación a las posibles ineficiencias solapamientos y duplicidades entre los sectores públicos tanto del sector público vasco como con el sector público estatal los socialistas destacamos estos dos cambios importantes es decir el de la simplificación de la administración

ambas cuestiones que podrán comprobar se han incluido a través de disposiciones adicionales y que responden al acuerdo de gobierno suscrito entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista en el que ya se señalaba que esta ley debe de evitar duplicidades y redundancias racionalizando y simplificando todo el entramado de empresas y sociedades públicas y voy finalizando señorías hoy hay ya una necesidad reconocida también por las instituciones vascas de recuperar la confianza en la red pública

que reclaman los tiempos actuales y también la sociedad una cultura que se basa en la eficacia y en la eficiencia en la organización y en la gobernanza en la transparencia

ciudadana y por eso tal y como he dicho al inicio de mi intervención con esta proposición pretendemos completar el camino emprendido en pasadas legislaturas con la aprobación

de conducta del cargo público con el de régimen de incompatibilidades y con la ya presentada y mencionada ley sobre transparencia que se va a debatir de forma paralela a esta ley

euskal sektore publikoari buruz eta aurkezteko arrazoiak azaldu nahi ditugu gaur la proposición de ley del sector público vasco que hoy traemos para su toma en consideración sigue el camino ya trazado en la anterior legislatura tanto por el gobierno vasco como por este parlamento tiene como antecedente el proyecto de ley de la administración pública vasca aprobado en septiembre de dos mil catorce por el gobierno vasco y retirado por este

por el contexto político negativo y toma como base el proyecto de ley en esta materia que

retomamos ahora este proyecto adaptado y enriquecido

grupos parlamentarios ambos grupos hemos visto la oportunidad de proseguir con este trabajo y de agilizar asimismo el ritmo legislativo de esta cámara la proposición de ley del sector público vasco viene a cubrir una laguna normativa importante en euskadi la actual

antigua y claramente insuficiente para afrontar los retos del nuevo modelo de gobernanza pública desde que en mil novecientos ochenta y uno se aprobó la ley de gobierno euskadi necesita

que recoja las líneas generales de nuestro régimen jurídico de organización y de funcionamiento parcialmente esta necesidad en parte se ha cubierto con la ley de principios ordenadores de la hacienda general vasca

completamente esta materia si miramos por ejemplo otras comunidades autónomas o el mismo gobierno del estado junto con la ley de gobierno disponen de una ley

debido a diversas circunstancias no disponemos de una ley propia en esta materia urge por tanto articular debidamente las bases sobre las que asentar nuestro sector público y así responder de una manera más eficaz y más ágil a las necesidades de la ciudadanía ciudadanía que es cada vez más exigente con lo público somos una sociedad compleja diversa políticamente plural e institucionalmente articulada en distintos niveles por ello nuestro modelo de gobernanza pública debe asentarse en un sector público

relacional inclusivo y que opere en red y además asentarse sobre los principios de eficiencia eficacia transparencia evaluación

es por ello que queremos un sector público comprometido con el derecho a una buena administración en cuanto al carácter de la ley la proposición de ley del sector público vasco en gran medida tiene carácter programático es un texto

y que promueve un cambio cultural progresivo de modernización de todo el sector público sector público entendido este como el conjunto de administraciones públicas organismos autónomos entes públicos de derecho público y privado sociedades públicas y demás

de los que se valen los distintos niveles de gobierno este país el autonómico foral y local pero todo ello

el ámbito competencial de cada nivel institucional y sin agotar el espacio organizativo que corresponde a cada uno de ellos en segundo lugar esta proposición de ley

nuestro régimen jurídico cómo nos organizamos cómo ejercemos nuestras competencias cómo nos relacionamos con la ciudadanía a través de la administración electrónica eta gainera

en definitiva esta ley promueve y consolida nuestro propio modelo no pretende transformaciones radicales ni traumáticas y sí pretende continuar avanzando en un

ya iniciado un proceso alineado además con los paradigmas más modernos de la gobernanza europea y que además respeta nuestro sistema institucional básico

puedan diseñar su propio modelo organizativo en cuanto al contenido propio de la ley destacamos tres hitos el primero sería endurecer las fórmulas de creación

limitar la dimensión del sector público desde el partido nacionalista vasco creemos especialmente necesario el

y además sometidos a control político y evaluación y que esto todo está recogido en el artículo cuarenta y dos del cuerpo de la ley que además exige para su creación

la clase de entes así no se crearán nuevos entes si el interés general queda garantizado eficaz y eficientemente con los entes que ya disponemos y si se crearan nuevos

a reordenar lo que ya tenemos y además este círculo de control se cierra con la creación del registro de entidades del sector público de euskadi

de la vida de estas el segundo hito se trata de

para racionalizar y simplificar las estructuras administrativas en este sentido la evaluación debe resultar crucial

dotar de buenas y nuevas herramientas a nuestro ordenamiento jurídico para a través de ellas poder revisar lo que tenemos horregatik guztiagatik euskadik lege bat behar du

urge por tanto aprobar una ley sobre la que asentar nuestro sector público vasco urge impulsar

y que opere desde la perspectiva de la buena gobernanza y nueva cultura

gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días a todos el grupo popular ha votado a favor de la tramitación de esta norma porque entendemos que se trata

el gobierno presentó un articulado muy parecido al que los dos grupos proponentes nos han presentado en esta ocasión que compartía exactamente los mismos objetivos y puesto que colaboramos en su tramitación presentamos un numeroso grupo de enmiendas la mayoría de las cuales no han sido tenidas en cuenta por los grupos proponentes a la hora de

al comienzo de esta legislatura no obstante nos volveremos a poner a trabajar y a intentar mejorar este articulado que va a regir el sector público vasco que entendemos que es importante precisamente por el volumen de su actividad hay que tener en cuenta

actividad económica que conlleva el importante volumen de los presupuestos públicos que afecta todo el sector público vasco y sobre todo la gran cantidad de ciudadanos que trabajan para este sector público

entendemos que lo que el texto tiene que conseguir es ordenar organizar conseguir un registro de todos los entes que forman parte del entramado público

y de la aplicación de sus activos y sus pasivos cuando desaparecen y sobre todo repercusión social que tiene para conseguir que sea un instrumento al servicio del ciudadano y no un instrumento al servicio del gobierno de turno o un instrumento al servicio de partidos políticos en función de los cambios legislativos perdón de los cambios que puedan darse en los diversos procesos

para sentarnos a trabajar de inmediato y a colaborar con los grupos proponentes a los que les pedimos confianza sobre todo les pedimos confianza y en su equipo este proyecto de ley estaba dentro del calendario legislativo del gobierno yo no sé si ustedes han considerado que el gobierno

para cumplir ese calendario legislativo como ya vimos que ocurrió en la legislatura anterior y ustedes pues han roto esa cortesía parlamentaria y se han adelantado y han presentado

para evitar que lo tenga que hacer el gobierno entendemos que eso ocurre no para saltarse todos los informes preceptivos que este parlamento por ley

los informes de impacto económico los informes de la comisión jurídica asesora y otros tantos que tienen que venir de la mano de los proyectos que presenta el gobierno pensando que su único afán es que consideran que el gobierno no va a ser capaz de cumplir

que tenía el gobierno previsto presentar más adelante y ustedes se adelantan porque no confían

sí señora presidenta si me estoy explicando sí pero sin meterse con otros partidos si me abres turno

en que esas no eran las intenciones de los grupos proponentes nosotros desde aquí tendemos la mano al gobierno para futuros proyectos que no se vea capaz de presentar y para este en concreto a colaborar

mejorar el texto que hoy ha iniciado su tramitación parlamentaria muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

bai mila esker lehendakari andrea egun on guztioi en la toma de consideración de la proposición de ley del sector público vasco formulada por los grupos

y digo esto porque no parece que hayamos leído el mismo texto dicha abstención viene justificada por una serie de consideraciones que voy a pasar a exponer

es que creemos que dicha iniciativa debía de venir de la mano del gobierno en forma de proyecto de ley con los consiguientes estudios de impacto no solo económicos sino también medioambientales

la exposición de motivos de la proposición de ley afirma que se trata de mejorar la calidad legislativa de la ordenación de la administración del sector público de la comunidad autónoma vasca

en una mejora de la percepción de los ciudadanos respecto a la misma y entendemos que dicha formulación acompañada de esfuerzos por definir registrar interrelacionar someter a criterios de creación y funcionamiento

podría ser positiva no obstante encontramos que en aras

ha de hacerse un esfuerzo para referenciar normativa básica que también pueda ser

y también en la medida de lo posible ajustarse a estándares conceptuales separándose de ellos solo en la medida que una especialidad competencial o material

creemos que es frecuente la percepción de la ciudadanía de hallarse en un laberinto de difícil salida cuando tienen que manejarse en el entramado institucional del sector público vasco

ante algo más caótico que organizado y no digamos cuando además debe tener en cuenta una organización multinivel que utiliza términos distintos para hacer referencia

que esta proposición no de ley no cumple algunos requisitos necesarios en cuanto a sistematización claridad y calidad

además de establecer principios y normas comunes que sean aplicables al resto del sector público vasco lo hace de manera compleja y poco sistemática

y técnicas en gestión organizacionales y directivas de cualquier administración un verdadero texto de referencias que aporte coherencia a dicho

es a la regulación del régimen de evaluación cuya concreción queda relegada al desarrollo reglamentario y de la oficina de control económico esto conlleva

una verdadera dejadez en muchos aspectos relativo al control y a la rendición de cuentas

ni la eficiencia ni la transparencia ni calificar la gobernanza además de dificultar mucho la participación ciudadana en asuntos públicos del mismo modo

para acotar el fenómeno relativo a la huída del derecho administrativo y la práctica cada vez más habitual de las administraciones de operar a través de entes interpuestos que se escaparían a la aplicación del derecho administrativa en aras

de mayor flexibilidad y agilidad en la gestión de sus intereses

asuntos públicos esa falta de ambición de no atajarse a tiempo podrían amparar corrupción puertas giratorias y otros fenómenos no deseados

por la dosis de falta de transparencia con la que se les permite actuar y con especial indefensión del interés público el bien común y la ciudadanía por último mencionar desde el ámbito de municipalismo que la regulación de los artículos diez sesenta sesenta y uno sesenta y cinco sesenta y seis setenta setenta y uno y setenta y dos de la disposición adicional primera deben examinarse como no puede ser de otra forma desde el principio de autonomía local que tiene rango constitucional como ordenación territorial básica

hace que sea muy fácil malinterpretarlos en definitiva nos topamos con un texto posterior que despliega un efecto contrario una futura ley difícil de integrar entender o cumplir o que aumenta sin más

siendo esto un texto bastante común cuando la ley en cuestión se llena de propósitos y buenas intenciones en lugar de normas porque recordemos que la calidad legislativa es más un atributo de las propias normas y no de las buenas intenciones como decía al inicio de mi intervención nos hemos abstenido porque estamos abiertos al debate y acordar para la mejora de la futura ley del sector público vasco mila esker

izango balitz benetan hauek ez dira moduak legea legebiltzar honetara ekartzeko hoy una vez más tenemos sobre la mesa una ley una propuesta de ley que el gobierno se había comprometido a presentar una ley que estaba en el calendario legislativo de este gobierno y una vez más la tenemos presentado por los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno y vienen aquí y otra vez como hicieron con la ley de transparencia la presentan como una ley propia es verdad que con algunas frases de buenrollismo pero ley propia una ley

presentado por el gobierno y una ley que otra vez presentan como si fuera fruto del trabajo de dos grupos parlamentarios

una ley que como la ley de transparencia que presentaron contiene párrafos enteros escritos por otros grupos de este parlamento que no firman esta propuesta

estas no son formas estas son malos comienzos

que aparentemente es tan importante y digo que aparentemente es tan importante porque si el gobierno la introdujo en su calendario legislativo entiendo

es una ley importante pero la verdad no nos parecen maneras hacer dejación de la obligación de cumplir ese calendario legislativo que se autoimpuso el gobierno ninguno de los que estamos aquí se lo impusimos es un calendario

y deja que los grupos que lo sustentan lo traigan aquí al parlamento la verdad es que la excusa de agilizar el ritmo legislativo no es válida será

autojustificación pero no es una excusa válida el calendario legislativo está para cumplirlo y pedir responsabilidad al resto de grupos está

la última inspección realizada en la nuclear de garoña ha detectado el rastro de un antiguo vertido de cesio radiactivo junto al almacén temporal de bidones y residuos de la central que no se detectó en su momento

adecuadamente la contaminación fue hallada el veinte de junio durante una inspección rutinaria debajo de tres contenedores de hormigón sin moverse desde dos mil nueve

en el último acta de la reunión plenaria del csn beraz

han de empezar sin más demora no pase como valdellós que lleva cerrada desde el ochenta y nueve y no está desmantelada

y además ofrecer garantías de transparencia como ha aportado elkarrekin podemos a esta iniciativa que para garantizar una vigilancia activa en el proceso se cree una comisión interinstitucional que el plan de reactivación económica de la zona de garoña incluya a los municipios de araba incluidos en la zona de influencia de garoña

muy importante pedir desde este parlamento a que se proceda dando continuidad a la decisión sobre garoña al cierre del resto de las centrales nucleares del estado

el informe del estado de la industria nuclear dos mil diecisiete

y las conclusiones yo creo que no pueden ser más claras y leo algunas partes

es tal vez el documento más decisivo en la historia de la energía nuclear el informe lo deja claro y con detalle que el debate se ha terminado la energía nuclear ha sido eclipsada por el viento y por el sol tal vez la revolución no ha sido televisada pero se ha dado igualmente le energía renovable es más limpia y de menor costo

el mundo no necesita construir más plantas nucleares para evitar el cambio climático y desde luego mucho menos para ahorrar dinero nik uste honek

y esto hay que tener en cuenta a la hora de abordar el post

y debe quedar claro que la cosa no se acaba cuando se cierran las centrales nucleares y de hecho se avistan varios problemas la solidaridad intergeneracional y el principio de quien contamina paga nos obliga a no transferir los costes ambientales y económicos a las siguientes generaciones

la legislación europea se cumplirá para solucionar la cuestión económica se creó un fondo en mil novecientos ochenta y tres

y el plan el último plan general de residuos nucleares calcula que se necesitarán

de euros para financiar los desmantelamientos y los almacenamientos los temporales y el definitivo el almacenamiento geológico profundo que debiera estar construido en la década de los años ochenta de este siglo eso contando

de vida de las centrales nucleares porque si se amplia como quieren algunos el costo evidentemente aumentaría

de estos veinte mil millónes calculados se han gastado

la mayor parte en zorita y en vandellós y en el fondo hay ahora mismo unos cuatro mil millónes de euros cuenta fácil

en treinta y tres años se han recaudado nueve mil millónes y en siete se deberían recaudar

es evidente que no se va a cumplir el objetivo o visto en perspectiva la relación entre provisión de fondos y vida útil de las centrales es de europa occidental mientras la vida útil de las centrales esta alrededor del sesenta por ciento la provisión de fondos no llega al treinta por ciento lejos de europa occidental y esto lamentablemente tiene varios pero sobre todo un responsable político y es y se llama partido popular

bermatuko y esto no lo digo yo lo dice el tribunal de cuentas

que cito textualmente no estaría garantizado como requiere la normativa comunitaria que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas principio que inspira también la legislación nacional de protección del medio ambiente

obviamente nuestro grupo tuvo la satisfacción del deber cumplido pero no vamos a colgarnos esa medalla la medalla del cierre de garoña le corresponde a la ciudadanía de gasteiz de araba que en las calles consiguieron que se cerrase esta central nuclear no fuimos

el movimiento ecologista quien impulsó este cierre y por lo tanto quienes ahora se cuelgan las medallas

y los reconocimientos deberían reconocer a su vez que si actuaron

para cerrar la central nuclear ha sido cuando vieron la amenaza del consenso social la amenaza

en contra de una central que consideraban peligrosa e innecesaria

como digo garoña no era necesaria ni garoña ni el resto de centrales nucleares como ha dicho el señor otero la batalla por la energía nuclear está ganada la han ganado después de cuarenta años los movimientos ecologistas y la ha ganado la sociedad

sin embargo todavía permanece la batalla política

a nivel del estado español y aquí tenemos que decir que a pesar de que es preciso ya establecer un cierre planificado y ordenado de todo el parque nuclear español

tenemos algunos partidos encabezados por el partido popular que han actuado con una actitud irresponsable que ha llevado incluso a comprometer

de las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares sabemos ya sabe todo el mundo

y es peligrosa pero lo más peligroso de todo ello son los residuos radiactivos que nos van a quedar durante cientos y miles de años y hay que decir que aquí

tenemos un problema seguimos teniendo un problema y es que los residuos radiactivos de garoña ahora mismo están en una piscina y ya han advertido los ecologistas que es posible que haya barras de combustible rotas que hagan complejo y peligroso el traslado

temporal como el que se quiere construir dentro de la central por lo tanto es imprescindible como va a quedar reflejado en la declaración de hoy crear una comisión interinstitucional que asegure que supervise

como para el medio ambiente ese almacén temporal

porque por desgracia no va a ser un almacén temporal sino intemporal porque el almacén definitivo que debería estar construido en el estado español

y no hay perspectiva de que vaya a existir en los próximos años por lo tanto en garoña a pesar del desmantelamiento del núcleo de la central

por un periodo indefinido y terminaré mi discurso hablando del futuro de la comarca se ha dicho

es al contrario lo que ha hecho la energía nuclear es hipotecar el futuro de esos lugares para que se hagan una idea

solo hay mil que son los que viven de la central nuclear poco más ninguna otra actividad económica ha querido establecerse en ese valle

evidentemente será necesario hacer un plan de reactivación económica del valle para que recupere su actividad económica pero no alarmemos a la ciudadanía y sobre todo no alarmemos a los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo trabajan en la central los trabajos de desmantelamiento durarán como mínimo diez años y las experiencias que existen a día de hoy

va a triplicar va a triplicar el número de empleos que había cuando la central estaba abierta por lo tanto no hay riesgo para el empleo

que dentro de diez años o más ayude a desarrollar actividades no industriales sino ligadas a la vocación de ese valle y de los pueblos alaveses que lo circundan ecoturismo

y con valor añadido etcétera etcétera finalizo diciendo que desde elkarrekin podemos nos felicitamos como no pudiera ser de otra manera por el cierre de garoña

en favor de un control del desmantelamiento de la central de un control interinstitucional de que este desmantelamiento se haga de forma segura y

haya un plan de reactivación para la comarca pero no nos equivoquemos ya lo ha dicho el señor otero convendría que reconociéramos a día de hoy que el apoyo a la energía nuclear ha sido un error histórico que nos va a costar nos está costando ya caro a todos los lugares

señor otero no no me aburre yo

iniciativas a pesar de que sean reiterativas y a pesar de que estemos ante una de las iniciativas más que se han visto por aquí en los últimos tiempos supongo que algunos se vieron me da la sensación ciertamente frustrados con la decisión del cierre definitivo de garoña

no sé se llevaron una mala noticia el pasado uno

disgusto el gobierno de españa acababa de cerrar garoña el gobierno de españa acababa de cerrar garoña un gobierno del partido popular cerraba en españa

cerraba una central nuclear en españa es un panorama para algunos yo creo que tiene un panorama insoportable de contemplar un gobierno de españa un gobierno del pp cerrando una central nuclear

en ese sentido tenga que manifestar todas esas críticas al partido popular

en el sector nuclear de alguna manera pero el partido popular el uno de agosto cerraba definitivamente una central nuclear gobierno de españa lo cierto es que algunos

con la perspectiva con la seguridad además que tenían toda la seguridad y toda la perspectiva de que lo que iba a hacer el gobierno de españa el gobierno del partido popular era hacer todo lo posible por la reapertura de la central nuclear por convencer

el partido popular y cierra la central para siempre

comienza su desmantelamiento porque se dan los pasos necesarios en relación con las órdenes con las normas que están ahí con las decisiones que tendrán que venir

en ese desmantelamiento y cierre definitivo de la central

y eso causa frustración y hay que seguir hablando de un tema que ya está encarrilado porque

rápidamente pipi papa y luego pues bueno vamos a hablar de la

del gobierno en relación con la unión europea en relación con planes de energía

comisión de expertos que se crea energía está ahí en marcha pues bueno habrá cauces y se podrá hablar y aquí también se podrá hablar pero no no hoy el tema era

como un elemento de ariete político y además a no reconocer la verdad que es el partido popular y el gobierno del partido popular

no me aburre puedo proclamar que el partido popular y el gobierno del partido popular

y además tenemos que agradecer el papel fundamental de agentes como usted y su grupo parlamentario en el cierre

y ahora le tendremos que agradecer el papel en el control del desmantelamiento de garoña sin duda además lo iremos viendo porque nos irá presentando

una iniciativa parlamentaria que debatiremos a gusto no me aburriré y aprenderé más cada día de estas cuestiones enmienda de transacción

felicita a la sociedad alavesa y vasca en general podemos felicitar a la sociedad alavesa a la sociedad vasca a la sociedad castellano leonesa pero también tenemos que felicitar al gobierno de españa

yo he visto aquí un decreto u orden de uno de agosto donde se deniega la renovación de la autorización explotación y además se dan las cláusulas y las claves de cómo hay que proceder

igual esto todavía les cuesta más y habría que felicitar al señor sánchez galán

en este proceso final por qué no hay que ser exhaustivos a la hora de analizar y a la hora de hacer declaraciones pues mejor que seamos lo más exhaustivos posibles señor otero o sea se han dejado ahí algunas cuestiones han dejado algunas cosas claro que sí vamos a felicitar a

eso sí el parlamento vasco en el punto número dos se exige que sin más demora el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento

el procedimiento administrativo técnico y se han dejado uno y el laboral

vuelvo a decir hay que pensar mejor las enmiendas y las iniciativas parlamentarias

ya se han llegado a acuerdos con los trabajadores y además no hay más que leer

para darse cuenta de que han empezado ya las cosas de que se ha empezado ya a trabajar

en las relaciones con empresas en relación con los contenedores en lo que es el proceso el desmantelamiento es decir el proceso de desmantelamiento

también es innecesario que comiencen sin más demora no ya han comenzado otra cosa es que sigan que avancen que continúen pero comenzar sin más demora

en el punto número tres el parlamento vasco insta a garantizar la seguridad

por qué por la aplicación de las normas y por las aplicación de las leyes por las exigencias y por la profesionalidad del consejo de seguridad nuclear que garantizará ese proceso de desmantelamiento con la profesionalidad y la competencia de enresa por la propia nuclenor

credibilidad de cara a la promoción de la energía además por las leyes porque no hay más que leer la orden ministerial cuáles son las leyes que afectan sobre energía nuclear sobre creación del consejo de seguridad nuclear sobre el sector eléctrico sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas es decir una serie de reglamentos de protección sanitaria de radiaciones

que están ahí que se van a aplicar que son las que van a garantizar todo este proceso de desmantelamiento está claro que en ese sentido

se están dando pasos porque la construcción del ati la garantía en relación con los contenedores bueno pues así podrá seguir suficiente para usted

sobre la situación de hecho se está actuando ya señor otero se está actuando

parlamento vasco insta al gobierno vasco a la creación de una comisión

mejor serán los físicos nucleares los ingenieros nucleares los técnicos que

aborden ese proceso es decir es que el que más garantías me da a mí es decir

un ingeniero agrónomo de la diputación de álava y el alcalde de valdegovía

el consejo de seguridad nuclear y enresa no una comisión interinstitucional

esa comisión interinstitucional a mí no me da garantías me da garantías el consejo de seguridad nuclear y enresa

el parlamento vasco insta al gobierno de españa a ejecutar un plan que incluya los municipios vascos pues vamos a instar al gobierno vasco o a la diputación foral de álava

a que se involucre también y vamos a instarla también al gobierno de españa bien de acuerdo y además el gobierno de españa la junta de castilla y león ya están dando pasos en ese sentido yo creo que donde tenemos que estar pero póngale algo también algún deber al gobierno vasco póngaselo

es el que ha justificado un poco más el planteamiento que quería hacer que eso corresponderá yo creo que a otro debate el de la energía nuclear las centrales nucleares no estamos de acuerdo

unos pocos apuntes para intervenir porque este ha sido un tema

en los argumentos de los parlamentarios que me han precedido por tanto si me da la venia el señor barrio

de la necesidad virtud y que además incluso dentro de su dialéctica parlamentaria ha sido usted tremendamente habilidoso en el intento

que evidentemente por mucho que lo repita en esta cámara

haya hecho el intento pero permítame que le diga que no lo ha conseguido no lo ha conseguido entre otras cosas porque aquí se ha debatido

cuestión y todos conocemos el posicionamiento político que cada uno de los grupos parlamentarios ha tenido al respecto de este tema están los diarios de sesiones

están las actitudes y hoy venimos aquí al fin y al cabo

veníamos defendiendo durante muchos años yo que el señor galán hoy por la noche le llamaría para darle las gracias porque probablemente haya hecho usted una defensa muchísimo más vehemente de lo que él mismo pudiera hacer de la labor

por tanto qué quiere que le diga si la central nuclear de garoña se cierra

señora lópez de ocariz no señora lópez de ocariz es gracias primeramente a la presión social que los ciudadanos y ciudadanas de este país han hecho para que se cierre y señor becerra también a la presión que desde los diferentes grupos parlamentarios desde los diferentes grupos junteros y desde los diferentes grupos municipales

porque el papel de la política en esta cuestión también ha sido muy importante y tampoco

caer en el demagógico argumento de poner todos los huevos o todos los méritos en la cesta de los ciudadanos cuando aquí ha habido políticos que han estado dando la cara

va a ser una realidad lo sea por tanto reivindico el papel de los ciudadanos reivindico el papel de la política y de los políticos y políticas que han estado defendiendo el cierre de garoña no me diga que si se va a reabrir perdón que si se va a cerrar es gracias a ustedes entre otras cosas porque los que primero le pusimos

a esa central nuclear fue un gobierno socialista eso para empezar segundo porque si hubiera sido por ustedes esa central nuclear estaría reabierta

ha sido gracias a que las empresas que tienen la propiedad de esa central nuclear no han querido hacer las inversiones que querían si ustedes en esta cuestión lo único que han tenido ha sido una visión o un análisis de cuenta de resultados que le estaban cantando las empresas propietarias de garoña

la energía nuclear en esta cámara en el congreso de los diputados en el parlamento europeo

primero por la presión social segundo por la presión política y tercero porque las empresas explotadoras les han dicho que no iban a invertir ni un duro más qué nos está contando

es que su gobierno del que tan orgulloso está y me parece absolutamente legítimo aunque como comprenderá no lo comparto coja el toro por los cuernos y afronte los dos retos principales que tenemos en esta cuestión lehenengoa itxi

aurre egin landu eta martxan jarri esos son los tres principales retos que tenemos en estos momentos y nosotros desde el grupo parlamentario socialista

que se cree una comisión interinstitucional que analice que haga seguimiento y que fiscalice el cierre de la central nuclear de garoña a mí sí me da seguridad señor barrio se lo digo sinceramente y creo que es necesario por supuesto que sí

entre otras cosas porque no me fío de su gobierno por tanto creo que estamos ante tres retos importantísimos el primero

el segundo dar una alternativa y empezar a redactar desde ya

de dicha comarca reactivación social reactivación económica búsqueda de alternativas y en tercer lugar

un nuevo modelo energético lo decía el señor otero y estoy totalmente de acuerdo con él creo que se lo debemos a las generaciones futuras creo que el futuro

prolongar la vida de las centrales nucleares ni de este país ni de ningún lugar del mundo no voy a decir que haya sido un error probablemente en aquel momento en el momento que

en marcha ese modelo energético probablemente sería un avance a día de hoy es un absoluto atraso por tanto creo que en esos tres retos tenemos muchísimo trabajo yo le pediría a su gobierno que se ponga a la tarea ya menos flores y más trabajo entre otras cosas porque se lo debemos a todos los ciudadanos y ciudadanas

y a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir en seguridad y con un modelo energético mucho más sostenible eskerrik asko

erakunde arteko batzorde bat sortzea estamos otra vez con el tema de garoña y aunque parezca que es un tema retroactivo yo aplaudo la iniciativa señor otero porque me parece que hay que hablar del presente y del futuro y el presente y el futuro se llama desmantelamiento de garoña no se llama evidentemente

yo lo tengo claro y evidentemente creo que no fue el gobierno del pp

desmantelamiento y el desmantelamiento es una vez que se ha cerrado y es un proceso de futuro nosotros estamos de acuerdo en todos los puntos que hemos firmado pero yo destacaría uno importantísimo para mí

de que también nos vote si votamos por puntos esta pnl yo creo que es necesario una comisión por tres aspectos importantes el primero por el peligro del desmantelamiento hablamos de un desmantelamiento que puede acabar en el año dos mil treinta y tres un desmantelamiento que va a ser muy caro

y que no es como desmantelar una siderurgia o una industria química es una cosa mucho más peligrosa sobre todo para

en segundo lugar también es muy importante y creo que todavía nadie lo ha dicho en esta tribuna

que siempre ha acompañado al tema nuclear en general y al tema de garoña en particular tanto las empresas privadas propietarias de garoña como el consejo de seguridad nuclear

siempre han informado mal y tarde de cualquier elemento de cualquier incidente que había relacionado con garoña nunca han dicho la verdad a la primera más que gabinetes de comunicación eran gabinetes de desinformación para intentar tapar cualquier tipo de fisura que hubiera en la vasija nuclear en lugar de reconocer los incidentes que ha habido y por esto por este punto yo creo que es muy importante

que no dé como usted decía señor barrio garantías pero que sí de información en especial a los habitantes del entorno

pues por un puro derecho a la información tenemos que pedir esta comisión simplemente porque creo que los ciudadanos más de trescientos mil gasteiz incluida que viven en una área de veinte treinta kilómetros a la redonda de garoña tienen que saber

qué peligros tiene y creo que eso también choca con el segundo punto y es que hasta ahora nunca ha habido una política informativa seria

puede que haya gente que piense que es tirar las cuatro paredes y tirar el reactor y ya está

puede durar más de quince años que acabará en el dos mil treinta y tres y que va a costar trescientos millónes de euros y evidentemente también hay que decirles que hasta ahora

el año pasado y parece que va acabar al final del diecinueve hablamos de cantidades muy serias y muy fuertes para gente que vive en los entornos de las centrales nucleares

hablamos de que en vandellós había dos mil toneladas de material radiactivo y ya centrándonos en garoña tenemos que

que hay trescientos once toneladas de uranio dentro de la central

de material de residuos radiactivos la manipulación de todo esto es algo muy importante yo quiero insistir en que hay una diferencia es decir yo entiendo que todo el mundo en euskadi tiene derecho y tiene que tener información sobre qué pasa con garoña pero en especial esas trescientos mil personas a las que aunque el peligro grande se ha

todavía puede haber peligros con estas manipulaciones de elementos radiactivos tenemos una garantía y ahí estoy de acuerdo con el señor barrio y es que no lo van hacer el desmantelamiento las propias empresas sino que va a ser una empresa pública enresa

y que se va a ocupar de realizar este desmantelamiento esta es una garantía pero luego volvemos al segundo punto y el segundo punto es la opacidad informativa que es lo que yo antes decía nunca

bajar el grado de peligrosidad de cualquier tipo de incidentes y yo por eso no me fío yo por eso no me fío

ni de endesa en este aspecto me refiero en el aspecto de la información que han hecho

el que el gobierno vasco y diputación de álava ayuntamientos sociedad civil tengan una presencia en ese desmantelamiento

esa comisión lo que tiene que hacer es al resto de la población alavesa y vasca decir paso a paso cómo va

cuando hemos entrado a la cámara hoy a la mañana yo le he dicho y se lo sigo manteniendo que sí me gustaría que ustedes votaran que sí al cuarto punto al de la comisión hay que recordar que cuando todavía se sentaba javier maroto entre ustedes hace tres o dos años

de setenta y cinco el señor maneiro siempre nos fallaba entonces yo creo que es importante que hoy todos los parlamentarios votáramos ese punto no le hablo del resto de los puntos

cuarto que se refiere a la comisión creo que es interesante porque es defender los derechos

sino simplemente a la información el que haya una información fluida y el que si algún día ocurre algún tipo de incidente nos enteremos en el mismo día y no nos enteremos dentro de varios días yo creo que es fundamental

institucional alavesa y vasca en este asunto porque si no creo que estaríamos como en los últimos tiempos de garoña

que hasta ahora nunca ha habido una información fluida en este caso de garoña yo le animaría a que usted vote que sí a este cuarto punto

no queremos lograr garantías queremos que no haya opacidad informativa y queremos que

sepa mensual trimestralmente cómo van los trabajos de desmantelamiento y que sepan evidentemente

que este desmantelamiento va a ser ejemplar pero el hecho de que este desmantelamiento sea ejemplar que ojalá lo sea

garoña maravillosamente bien pero eso no quita para que una comisión hable con enresa y para que esa comisión informe de lo bien que va el proceso de desmantelamiento

para que esté informada día a día de los peligros o de los trabajos

el amplio acuerdo que hay en la cámara con este tema no pensaba

después de su intervención barrio no me queda más remedio que

si no fuera tan grave y tan serio todo lo relacionado con la energía nuclear y los problemas que hay encima de la mesa tanto en garoña como con el resto del parque nuclear

porque me parece que su intervención

pero sí le voy a felicitar porque es usted capaz de un tema tan serio y tan fuerte como este venir y hacer que el tema de garoña el desmantelamiento y la petición de la comisión interinstitucional

en ese sentido sí que me parece que es como para felicitarle venir aquí no atender a ninguna de las cuestiones que se le ponen encima de la mesa y repetir como un loro

el gobierno de españa yo lo que sí le pediría es que ante este tipo de iniciativas si va a tomar la palabra porque si no absténganse

irresponsable esa actitud y no solo con respecto a lo de hoy sino que me parece irresponsable que no tengan ni la mínima capacidad de comunicación dentro de su propio partido ya que ayer en juntas generales de álava

votó a una iniciativa gemela a esta votó que sí a la comisión interinstitucional que usted ha intentado ridiculizar diciendo que vamos a ir el alcalde de valdegovía no sé si ha hablado de naranjito pero solo le ha faltado decir que también iba a ir naranjito

a sus propios compañero de partido de juntas generales de álava que ayer votaron favorablemente a la creación de la comisión

interinstitucional así que no creo que tenga mucho más que decir

tampoco tenía intención de intervenir pero me alegro de haber iniciado nuestro discurso mi discurso

a que los partidos políticos no nos tenemos que poner ninguna medalla en este tema y me vuelvo a reiterar en ello no hay nada peor que los conversos en este tema los conversos son los partidos que hace treinta cuarenta diez cinco años seguían defendiendo la energía nuclear seguían defendiendo la prórroga de las centrales nucleares

y ahora cuando toda la sociedad alavesa se felicita van a la foto van a la pancarta y quieren salir en ella

es lícito que quieran salir pero tengamos un poco la humildad

de reconocer que quienes hace cuarenta años decían que la energía nuclear era mala era peligrosa era cara eran los cuatro ecologistas coñazo que estaban en la pancarta nadie de esta cámara posiblemente estaba en esa pancarta con ellos entonces no nos arroguemos eso señor barrio también le reconozco el mérito

sortear el toro pero no diga usted que la comisión interinstitucional es innecesaria porque está el consejo de seguridad nuclear ustedes

lo han convertido en un órgano en un organismo que ahora mismo no tiene ninguna credibilidad ni a nivel del estado ni a nivel europeo un organismo

que habían aprobado ellos mismos para beneficiar para intentar conseguir la reapertura de garoña

incluso con votos particulares de consejeros del consejo de seguridad nuclear hace que ese mismo consejo ahora mismo no tenga la credibilidad que debería de tener para supervisar el desmantelamiento por lo tanto me reafirmo en que esta central nuclear

la han cerrado los colectivos ecologistas me alegro de que a día de hoy reconozcamos su mérito pero no nos pongamos a su altura porque no los partidos políticos incluso el mío que no existía en su momento no hemos estado a la altura

grave y serio no creo que sea como defienda yo la actitud de mi grupo y de mi partido en relación con el cierre de la central nuclear de garoña

son muchas cosas de las que usted forma parte primero la actitud enfermiza con el gobierno de españa con el gobierno del partido popular

que el partido popular es el responsable que el partido popular que el partido popular yo bajo luego

me defiendo y le digo las cosas como han sido

que no le he contestado como yo debía de contestar yo he hecho la defensa que tenía que hacer

el gobierno de españa que es del partido popular ha cerrado la central nuclear de garoña pero de todas maneras grave y serio es que usted forme parte de un partido que

yo recuerdo ahora al ingeniero ryan de la central nuclear de lemóniz

ni su partido todavía han condenado su asesinato grave y serio

garoña se cierra por la presión social garoña se cierra por la presión política y garoña se cierra

se empeñó en dejarla abierta durante un tiempo

pues se ha cerrado porque él se empeñó en dejarla abierta o sea que en ese sentido pero eso todo el mundo lo sabe y lo hemos hablado aquí muchas veces no sé yo habré intervenido en esta cámara sobre garoña pues no sé veinte veces y efectivamente

en relación con sus situaciones sus vicisitudes y en relación con lo que ha ido pasando así que en ese sentido yo creo que hay ser un poco más humilde efectivamente vamos a repartir los méritos no vamos a hablar de manera objetiva y sí que es cierto yo también estoy de acuerdo vamos a hablar

qué pasos vamos dando y efectivamente podemos discutir sobre cuestiones como la comisión de seguimiento

cuestiones así pedir al gobierno garantías pues sí pues y al consejo de seguridad nuclear pues también

su vida energética cuando la podían haber cerrado y eso es lo que pasó

dramatizar tanto con esa cuestión y vamos a reconocerlo y ya está el señor ramírez escudero me habla de la comisión de seguimiento

pero si todos los grupos de esta cámara tienen diputados en el congreso de los diputados solicitudes de información

comparecencias de los ministros comparecencias de los directores generales comparecencias del presidente del csn del presidente de enresa pues para que digan para que expliquen en cada momento para que sean transparentes que lo son porque no hay más que ver las páginas web y ver los informes que se publican en cada paso que se da

la información no hace falta una comisión de seguimiento con un alcalde con un diputado general con una consejera y con una serie de técnicos que además no son expertos en la materia no hace falta buen o pues si se crea que se cree bien pues ya está pues otro canal más de

con las iniciativas parlamentarias ante el gobierno ante el consejo de seguridad nuclear señor becerra y

de que se dará porque el gobierno tiene obligación es además es que estamos avanzando mucho en la transparencia en todos los gobiernos y en todas las instituciones y en el consejo de seguridad nuclear y en enresa también porque estamos viendo leemos sus páginas webs y vemos sus informes

de garoña y las vicisitudes últimas lo hemos visto muy claro y

becerra hablaba de la falta de credibilidad del consejo de seguridad nuclear

qué personas trabajan ahí qué comisiones técnicas tienen para que usted bueno hablaba usted del consejo y de las lagunas decisiones políticas algunos votos particulares

para que vea la solvencia y la capacidad que tiene y el contraste internacional que tiene un consejo como

porque es ciertamente insuficiente además

a la hora de valorar pues también habría que valorar las decisiones de quienes han cerrado la central nuclear

vamos a hablar de la presión vamos a hablar de los políticos de los partidos volvamos a hablar del gobierno también de españa es que

y la justifica y además pone en marcha el protocolo de desmantelamiento en relación con las

aspecto laboral se han dado pasos en la central nuclear en relación con los trabajadores y con su futuro vamos a apreciarlo y vamos a decir que en las cuestiones del seguimiento y de la información pues también se van dando pasos y además es que esta en nuestra mano

sobre el futuro del desmantelamiento de la central nuclear en el congreso de los diputados el gobierno está obligado a responder y responderá muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko presidente andrea mire señor becerra voy a coincidir con usted en que yo tampoco me fio de los conversos

sobre todo de esos conversos que venían a la política sobre todo esos conversos que venían a la política a cambiarla y a las primeras de cambio

que quería prorrogar garoña se quedará gobernando

en esta cuestión en el partido socialista conversiones

que la primera moratoria que se firmó con fecha de caducidad la firmó un gobierno socialista presidido por felipe gonzález eso lo primero eso lo primero por tanto

ha mantenido la misma argumentación la misma línea argumental y la misma posición política y sí

garoña pero con fecha de caducidad sin vuelta a atrás en el dos mil trece reconózcalo señor barrio que no por mucho repetir las mismas cosas la gente se lo va a creer

que sus medias verdades ya no cuelan que en esta cuestión la cosa está meridianamente clara por mucho que quieran decirlo que sí que ha habido votos particulares en el consejo de seguridad nuclear en contra de la prorroga de garoña

dígalos señor becerra dígalo no tenga complejo que nosotros hemos sabido estar detrás de la pancarta y en las instituciones haciendo política ojala que ustedes algún día

y que además de estar detrás de una pancarta se puede venir aquí a hacer política para mejorar la vida de esos ciudadanos ojala que puedan aprenderlo algún día

gracias a ustedes pues igual también se lo tendremos que agradecer oiga pero permítame una cosa yo tengo la conciencia muy clara de que los míos siempre estuvieron desde el principio

isiltasuna bueno los cuatro parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra parecían con perdón

que garoña se ha cerrado ya que es historia es decir que ya garoña está cerrado que queremos seguir hablando de quién cerró

el tema de quién cómo cuándo dónde y por qué cerró garoña y vamos a hablar del desmantelamiento que es lo que nos traía hoy a esta cámara yo señor barrio usted decía como que sospechábamos de que

tengo fe cómo no en la posibilidades técnicas de iberdrola pero lo que no tengo fe

de estos organismos usted dice que siempre se ha informado yo le puedo decir que no que siempre ha habido unas ganas de postergar la información unas ganas de disimularla la información siempre que esa información fuera en contra evidentemente de nuclenor

esa comisión que creo que es necesaria y que le sigo invitando a que vote en el número cuatro aunque no vote en lo demás yo solo le pido no por garantías técnicas porque evidentemente en esa comisión no va a estar

yo no es por garantías técnicas de las que evidentemente no sabemos mucho es por garantías puramente informativas

tengamos una información aparte de la que usted ha dicho del parlamento y demás del congreso que tengamos una información

labores de desmantelamiento yo estoy con usted en que pueden ser un ejemplo de desmantelamiento pero estaría bien

para celebrarlo y si es malo para intentar ejercer algún tipo de control no ha aportado usted ninguna razón lógica para votar que no a esa comisión

para solicitar el apoyo de esta cámara a una iniciativa que consideramos

económico y social del territorio histórico de gipuzkoa para garantizar la viabilidad presente y futura

pero también para el desarrollo económico y social del conjunto de euskadi

hemos debatido sobre este aspecto en esta cámara ya sea en el pleno pero también en comisión llevamos años debatiendo en torno a las características y funcionalidad del aeropuerto de donostia en hondarribia y por lo tanto todos conocemos también los extremos sobre los cuales estamos debatiendo o vamos a proceder a debatir sobre esta materia amén de que los condicionantes y las características técnicas

se puedan resolver en muy poco tiempo y en muy pocas frases como ustedes saben los avatares que han aquejado al aeropuerto

vienen siendo desde el año dos mil uno ciertamente complicados

el origen que nos ha traído hasta aquí es que la normativa internacional de seguridad

operar para que determinadas aeronaves puedan operar en aeropuertos

desde el año dos mil uno ha sido objeto de debate sobre la dimensión de su pista

que planteaba la ampliación de la pista para garantizar esa operatividad en la adecuación a las normas de seguridad levantó una polémica en el territorio histórico de gipuzkoa y también en el conjunto de euskadi una polémica que llevó a que

del plan director o más concretamente de las previsiones de la ampliación de la pista contempladas

desde el año dos mil uno han pasado muchas cosas ha habido muchos debates unos y otros nos hemos pronunciado y lo que parecía que era pacífico

una mayoría de fuerzas política la idoneidad de una ampliación de la pista no

del año dos mil uno sino ampliación más contenida y más controlada en su dimensión

al parecer un pronunciamiento político en el cual todos compartíamos resulta que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo y han ido cambiando las posiciones

señor andueza no tengo una especial animadversión por los conversos todo

y en este caso la conversión de algunos ha sido a peor a peor porque dar la espalda a esta infraestructura es condenarla

o no pero lo que sí es verdad es que si no se toman medidas para garantizar esa operatividad podemos prescindir y podemos llegar a prescindir

importantísima para nuestras empresas para nuestros emprendedores y para nuestros ciudadanos para nuestra economía en definitiva y por lo tanto para nuestro bienestar y para nuestro progreso

invasiva en el territorio una infraestructura que requiera de una inversión desproporcionada sino de lo que estamos hablando es que ya tenemos una infraestructura tenemos una infraestructura que es exitosa

que gipuzkoa se pueda conectar con el resto de españa de una manera muy ágil y muy eficaz ha permitido el movimiento como les decía antes de empresarios y de emprendedores y ha permitido también que nuestros ciudadanos puedan moverse con más opciones y ha permitido también que otros puedan venir a nuestro territorio por lo tanto es una infraestructura útil

convenir todos pero la sorpresa es que

fruto de esa normativa internacional de seguridad

recorte de la pista ciento cincuenta metros por cada cabecera que provocaron posteriormente que el ministerio de fomento

a través de una fórmula que algunos han calificado como parche yo no creo que sea tal pero sí que es una fórmula que soluciona que sale al paso del riesgo

y que probablemente finalice según los planes establecidos por el propio ministerio de fomento y por la adjudicación de la contrata finalice este mismo año

esta obra esta obra de ranurado no garantiza que el airbus trescientos diecinueve que es fundamentalmente el avión

cuya operatividad se garantiza con la ampliación de la pista pueda seguir operando a presente y a futuro con lo cual si

en el aeropuerto también seguiremos provocando y manteniendo un monopolio que en estos momentos ejerce una compañía monopolio que ejerce una compañía que además impone

que impone unos precios de los billetes de avión realmente desorbitados cualquiera que tenga la oportunidad o intente volar desde el aeropuerto de hondarribia sabe

a madrid que a new york en muchas ocasiones y esto es un dato objetivo usted puede comprar un billete

y sale más barato que volar a madrid y esto

y la medida para acabar con esta situación porque tenemos aquí operatividad seguridad desarrollo económico y social pero también

la ampliación de la pista que se plantea y que hasta hace poco compartíamos al menos el partido nacionalista vasco el partido socialista y el partido popular hasta hace poco digo que el año dos mil nueve

compartíamos la idoneidad de la ampliación de la pista garantiza la operatividad

esto no es un tema menor garantiza los puestos de trabajo saben ustedes que en estos momentos

la normativa de seguridad impone también determinadas normativas de seguridad obligan a que existan veinte bomberos por ejemplo

si no opera el airbus trescientos diecinueve pues con ocho bomberos sería suficiente porque

el nivel de exigencia de seguridad amén por supuesto de los empleos indirectos y de la actividad que hay complementaria al aeropuerto mejora la seguridad

no impone ninguna afección añadida a la que ya existe para los vecinos

de ciento cincuenta metros en cada cabecera o de cincuenta y ciento cincuenta en cada cabecera de pista

solo tiene beneficios el ministerio de fomento que es el responsable y quien tiene la competencia para efectuar

y el ministerio de fomento ha dicho oiga queremos hacer la ampliación de la pista pero esta ampliación de la pista la abordaremos si existe acuerdo interinstitucional en euskadi si el gobierno vasco si la diputación foral de gipuzkoa y los municipios de la zona están de acuerdo

es que pidamos al gobierno vasco que lidere entre las instituciones vascas

el respaldo a la ampliación de la pista y que ese

y que fruto del liderazgo del gobierno vasco al menos que lidere esto fruto de ese acuerdo el ministerio de fomento proceda a efectuar la ampliación de la pista

ustedes han enmendado creo que hay una enmienda de transacción acordada entre el partido nacionalista vasco partido socialista y podemos

pero déjenme también que les recuerde y su enmienda ya les he dicho en mi intervención

carece de fundamento porque los aspectos en los que ustedes plantean

solo se garantizan garantizando la viabilidad del aeropuerto

en ese sentido la seguridad de los viajeros y vecinos de la zona es una obviedad

cuando las condiciones de seguridad derivadas de la ampliación de la pista son efectivas y la operatividad presente y futura a la que ustedes apelan solo se garantiza

no afecta a las viviendas ya existentes como en el pasado se encargó de recordar algún consejero de esta cámara pero miren y especialmente

que haya enmendado en este sentido el partido socialista porque el veintisiete de septiembre de este mismo año es decir hace

que decía lo siguiente un acuerdo en comisión de fomento y decía que instaba al ministerio de fomento y aena

en los que se analicen todas las alternativas posibles incluida la ampliación incluida la ampliación yo tengo la sensación de que

de otro tipo de consideraciones lo que no existe es voluntad de garantizar que el aeropuerto de san sebastián

yo no creo que ustedes lo quieran cerrar pero creo que a ustedes no les importa que se cierre y tengo la sensación de que lo que a ustedes no les importa que se cierre primero porque es un aeropuerto que está en gipuzkoa

y no les importa que se cierre porque es que en su cosmovisión del mundo y ahí

muy hábilmente al partido socialista el aeropuerto que debe dar servicio a los guipuzcoanos es el de biarritz y nosotros estamos radicalmente en contra

desperdiciar el hecho de tener ya una infraestructura de estas características en gipuzkoa creemos que el mundo se ha convertido en un lugar tan competitivo en el que tener infraestructuras aeroportuarias es importantísimo y es fundamental en el que creemos que el flujo y dar posibilidad

creemos que dar la oportunidad a nuestras empresas también de tener más vías de comunicación y de transporte es positivo nosotros creemos que el progreso que permite un aeropuerto y las posibilidades de movilidad y de progreso económico

por tanto yo les pido que reconsideren su posición y

aunque fuera de una manera remota de la ampliación como algo factible porque la ampliación de la pista es como les digo lo que garantiza la viabilidad del aeropuerto

la ampliación de la pista es la que garantiza los puestos de trabajo del aeropuerto y esto es muy importante hay muchas familias que dependen del aeropuerto

muchas familias muchas familias y que garantiza también que nuestro territorio sea un lugar atractivo para inversores para empresas y también para quien nos quiere visitar y conocer

están preservadas se garantiza que no existan a través de los estudios de impacto ambiental pertinentes los vecinos no están afectados ya tienen una cabecera de pista no afecta a viviendas afecta a una villa de la zona de mendelu

en la que no existe ninguna actividad ni tan siquiera económica es decir la ampliación de la pista

es un buen negocio para los trabajadores es un buen negocio para nuestra empresa y es un buen negocio para gipuzkoa yo les pido que reconsideren

en este aspecto su enmienda y que introduzcan porque estamos a tiempo la posibilidad de la ampliación de la pista como una hipótesis factible a tener en cuenta para el futuro si no quieren pedirle al gobierno vasco que lidere algo en este país no lo hagan

un acuerdo interinstitucional en defensa de una de nuestras infraestructuras fundamentales no lo hagan pero introduzcan en su enmienda al menos la posibilidad de que la pista del aeropuerto se pueda
ampliar muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

la solidaridad de nuestro grupo con la vicepresidenta de la generalitat valenciana que ha sufrido esta noche un asedio de un grupo de extrema derecha en su propio domicilio lo cual nos parece algo absolutamente grave y condenable y entrando ya en la cuestión

no estamos de acuerdo con la iniciativa que trae el señor sémper

en la que fundamentalmente lo que se pide o lo que se busca es precisamente la ampliación de la pista del aeropuerto de hondarribia del aeropuerto de donostia san sebastián como

a que se amplíe la pista de este aeropuerto es una posición que llevábamos

no cabía lugar a dudas en cómo nos teníamos que posicionar ante esta iniciativa y además es una posición

yo también creo que a veces cuando se cambian posiciones no necesariamente tiene que ser malo puede haber evoluciones puede haber cambio de opiniones respecto a cosas pero sí es verdad que

siempre se ha mantenido contraria a la ampliación de este aeropuerto y creemos que no ha cambiado nada en lo fundamental de nuestros argumentos y de los argumentos con la coalición de elkarrekin podemos desde que se incluyeron en nuestro programa electoral

la votaremos en contra planteamos una enmienda

un acuerdo que entendemos que preserva esta posición que nosotros defendemos contraria a la ampliación de la pista del aeropuerto

el debate sobre la ampliación del aeropuerto es verdad que tomó especial forma a raíz de la obligación que tenemos de cumplir la normativa europea en materia de seguridad porque ese aeropuerto que tiene unas características

no las cumplía y nuestra organización desde hace muchos años desde hace una década venía pidiendo que se implantasen esas medidas de seguridad necesaria durante mucho tiempo durante demasiado tiempo se alargó ese debate

mostraron una actitud en mi opinión irresponsable de expresar que había que intentar retrasar lo máximo posible eso o incluso de no aplicarlo cuando estamos hablando de medidas de seguridad

europea sino porque son medidas de seguridad que

la vida de las personas finalmente efectivamente este año se están llevando a cabo

esas medidas de seguridad y nosotros pensamos

no tiene las consecuencias que nos plantea el señor sémper nosotros pensamos que si se hacen las cosas bien la viabilidad del aeropuerto de onyarbi es perfectamente ejecutable y nosotros y lo digo claramente no estamos ni por el cierre ni por dejar morir esas instalaciones nosotros queremos y creemos que es bueno

a la ampliación de las pistas tiene una argumentación que yo no me voy a alargar porque es creo de sobra conocida y que se basa fundamentalmente en las afecciones ustedes niegan esas afecciones nosotros afirmamos que esas afecciones existen y tienen cierta gravedad

el aeropuerto de onyarbi está en mitad dentro del territorio de hondarribia pero está en mitad entre onyarbi e irun en mitad de una población grande de más de cien mil o dos poblaciones grandes en conjunto más de cien mil habitantes que junto con hendaya es un núcleo

está en la mitad y además está en el entorno de un espacio especialmente protegido que usted conoce perfectamente y esa ampliación

que aquella que se planteó en sus inicios afecta gravemente a ese espacio que es un espacio especialmente protegido de paso de aves migratorias y que con la ampliación del aeropuerto sí se vería gravemente afectado y usted ha hecho referencia a los informes de impacto medioambiental no sé a cuáles

complicado conseguir informes favorables de impacto ambiental

estuviéramos todos de acuerdo en ampliarla no sería tan sencillo pero ya digo nosotros nos oponemos a esa ampliación porque va a tener unos negativos que no podemos aceptar de ninguna manera y porque creemos además que hay una alternativa posible que es no solo la de mejorar el aeropuerto de onyarbi sino la de mejorar todas las infraestructuras aeroportuarias de euskadi

hemos hecho incidencia en la transacción a la que hemos llegado a un acuerdo coordinarlas y hacer nuestro aeropuertos complementarios tenemos tres aeropuertos en la comunidad autónoma en un entorno de no demasiados kilómetros

realmente cerca del aeropuerto de san sebastián y el aeropuerto de pamplona también en una distancia corta por lo tanto pensamos que gestionando bien esto podemos tener un aeropuerto de hondarribia san sebastián perfectamente viable y que además no ponga en riesgo los puestos de trabajo a los que usted

que usted hoy se erija aquí también en defensor de los trabajadores y además de este sector concreto cuando ustedes no han tenido ningún pudor en hacer privatizaciones

han privatizado y externalizado la parte de este sector que podía dar y daba beneficios y en el sector público la parte que no podía dar beneficios que se coma eso el estado bien

y en este sentido tanto los municipios como diferentes instituciones sí que parece que están también en contra de la ampliación

diga que es necesaria esa ampliación ni tan siquiera para que

tampoco con partido nacionalista vasco y con partido socialista si entendiesemos que queda abierta

somos claros nos oponemos a la ampliación de la pista del aeropuerto por las razones que le he dado lo que sí creemos es que hay que planificar en esa transacción a la que hemos llegado se pide también las competencias creemos que eso es bueno para que planifiquemos efectivamente la actividad aeroportuaria

en euskadi nosotros como decía mantenemos una posición coherente en el tiempo desde hace

llevo oyendo esta cuestión desde hace mucho tiempo y siempre hemos mantenido la misma posición yo me alegro

que efectivamente tienen ya una posición clara y unánime en sus organizaciones contraria a la ampliación del aeropuerto porque sí que es verdad

opiniones contradictorias en el tiempo y muchas recientes tanto de miembros del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi muy recientemente denis itxaso se mostraba partidario en cambio marisol garmendia los dos miembros del mismo equipo de gobierno y del mismo partido

también se ha mostrado en alguna ocasión partidario y el señor eneko goya recientemente ha dicho que no y yo entiendo que la posición hoy del partido socialista es contraria a esta ampliación de la pista sino entiendo que no hubiera firmado esa transacción pero me preocupa escuchar a odón elorza que se mantiene

y en el pasado también el señor arriola se ha manifestado partidario de esto a mí sí me gustaría que eso quedase meridianamente claro y porque yo no lo digo hoy no lo estoy diciendo

no no señor andueza se lo digo sinceramente no lo estoy haciendo como reproche

en esta cámara quede claro que hay una mayoría en la que solamente no está el partido popular que mostramos nuestro rechazo a la ampliación de la pista del aeropuerto

de los partidos simplemente que quede claro no estoy utilizándolo como arma arrojadiza ni de reproche

que quede clara que la posición mayoritaria en euskadi es de que no se amplíe

por las diferentes razones que cada uno de los grupos vamos a dar la transacción que creo que se va a aprobar no es desde luego la iniciativa que nos hubiera gustado a nosotros ni usa el lenguaje a nosotros nos hubiera gustado y que creemos que hubiera sido más claro

en relación también a coordinación a nivel europeo que me parece que es importante no pasa nada

que nos oponemos a la ampliación de esa pista del aeropuerto porque está en un sitio muy especial y tiene unas afecciones graves

tanto unos como otros evitaran interpretar o evitaran poner en boca de los socialistas lo que décimos o lo que dejamos de decir

de respeto y si hoy estoy aquí interviniendo en esta cuestión es por un doble motivo primero porque soy el portavoz del ramo y segundo porque soy el secretario general de los socialistas guipuzcoanos

que es lo que va a valer dicho esto y esperando que no haya sonado arrogante qué poco sentido del humor tienen hombre

no pretendan posicionarnos de un lado o del otro porque hay términos medios

sea prudente porque creo que cabe la prudencia en esta cuestión hoy creo que el partido popular se está convirtiendo en un valedor tremendo del gobierno pero a mí me sorprende que hoy el señor sémper haya salido aquí a defender con tanta vehemencia una ampliación que sin embargo cuando escaso quince días le preguntaron por dicha ampliación

fue precisamente prudente no se pronunció al respecto de la no quiso pronunciarse al respecto de la ampliación y me pareció acertado y además lo comparto por qué

tendremos la posibilidad de comprobar si las obras de ranurado del aeropuerto de dan el resultado correspondiente y si la operatividad de ese aeropuerto

a esas obras por tanto permítame que hasta que yo no conozca el resultado de esas obras la efectividad de esas obras de esas mejoras

a decir que la única salida para el futuro de ese aeropuerto es la ampliación cuando quizá no haga falta si vemos que las obras

qué otras alternativas hay no vamos a cerrar ninguna puerta

entre otras cosas porque para acometer esa obra que usted ha puesto aquí encima de la mesa y para la que pide el apoyo de esta cámara

hacen falta unos informes medioambientales que probablemente pues en fin un resultado yo no voy a aventurarme a decir lo que pudieran o no decir esos informes porque no soy técnico medioambiental usted ha asegurado que

yo admiro que usted tenga conocimientos técnicos medioambientales mucho más superiores que los míos yo prefiero ser prudente de verdad se lo digo prefiero ser prudente en cualquier caso no quiero que nadie ponga en duda que los socialistas guipuzcoanos los socialistas vascos

de ese aeropuerto como una infraestructura estratégica para nuestro territorio

nosotros tenemos muy claro que la operatividad el futuro de ese aeropuerto tiene que ir principalmente garantizado por tres cuestiones la primera evidentemente la seguridad de los viajeros y de los vecinos de la zona el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales en condiciones óptimas y tercero la preservación del medio ambiente y el respeto a los planeamientos urbanos de las ciudades afectadas creo que es una cuestión de mínimos es lo mínimo que se puede pedir por tanto nosotros la operatividad la queremos apostaremos por esa operatividad

que se tienen que respetar sí o sí también le digo otra cosa en fin estamos hablando de una inversión que considero que es importante pero tampoco nos podemos olvidar que en la actualidad hay otras inversiones dentro de esa infraestructura que pueden acometerse

de los servicios que dé ese aeropuerto y que casualmente en los últimos tres años ese aeropuerto haya visto que se haya quitado hasta el cajero automático

por qué no empezamos por acometer inversiones que verdaderamente hagan de ese aeropuerto un aeropuerto óptimo y a la altura

mejorando ampliando los servicios y la oferta de las instalaciones atendiendo a las demandas que entre otras instituciones vienen realizando

varias instituciones afectadas por qué no abordamos esas inversiones por qué no

entre otros de los trabajadores que han sufrido por los recortes del gobierno del partido popular incluso que se haya puesto en riesgo su propia integridad física

de comisiones obreras en una comparecencia que hicieron en juntas generales hace creo recordar que unos dos o tres

por qué no empezamos por lo más sencillo por lo más básico para que verdaderamente ese aeropuerto sea competitivo y sea como decía un aeropuerto

usted en su legítimo juego político haya venido aquí a intentar sacarnos los colores intentando ver las contradicciones que tenemos

ver primero las de su casa porque su ministro ha sido tremendamente prudente cuestión o me da la sensación que ustedes han traído hoy aquí para evitar una responsabilidad y que la responsabilidad se reparta de forma alícuota entre diferentes instituciones y no la responsabilidad es de su gobierno la responsabilidad es de aena por tanto si ustedes

para garantizar el futuro del aeropuerto de hondarribi es la ampliación

que directamente aena encargue un proyecto de ejecución lo ponga encima de la mesa para que se valoren entre otras cosas las afecciones medioambientales y urbanísticas

lo pueden hacer tranquilamente no le hacen falta ni el aval de este parlamento ni el aval de las juntas generales

sus espaldas como decía repartiendo una responsabilidad de forma

en fin creo que en esta cuestión cabe la prudencia creo que estamos a tiempo de esperar cuáles son los resultados de las obras que se están acometiendo

a eso tomar las decisiones oportunas si fuera necesario desde luego para garantizar en todo caso el futuro y la operatividad plena del aeropuerto

behar dira y nos habla de liderazgo y yo también en ese sentido le diría lidergoa dela espainiako gobernuari

izan beharko zen bezala nosotros insisto que pretendemos por supuesto garantizar la viabilidad presente y futura la operatividad presente y futura del aeropuerto de hondarribia donostia y yo

entrar en las manifestaciones del partido socialista pero si el señor andueza me lo permite

de unas declaraciones muy recientes precisamente de la responsable en materia de infraestructura marisol garmendia de la diputación de gipuzkoa que dice

garantiza que todos los trabajos de ranurado se harán realidad

y que todo ello posibilitará garantizar la actual operatividad de las aeronaves y la diputada garmendia añade

así como las compañías más afectadas nos han asegurado y garantizado que con el ranurado de la pista que es una medida excepcional que han implementado por primera vez en hondarribia va a ser suficiente

nosotros confiamos en todo ello yo creo que su postura permítame que se lo diga suena un poco a pose

y siendo usted no solo parlamentario sino presidente del partido popular de gipuzkoa quizá el que debería de ejercer un cierto liderazgo es usted mismo

empezando por el concejal que tienen en el ayuntamiento de hondarribia que está en contra de la ampliación y por tanto en contra de sus planteamientos es decir en contra de los planteamientos del presidente del partido popular de gipuzkoa

probablemente en el ayuntamiento de irun porque como usted sabe dentro de las afecciones urbanísticas que tendría la ampliación de la pista

sería una afección a todo el polígono o la zona de san miguel anaka

concejal de urbanismo del ayuntamiento de irun y que desde hace muchísimos años el consistorio irundarra trata de desarrollar para poder ofrecer

muchas de ellas de protección oficial desde ese punto de vista usted debería de saber que en enero del año dos mil quince se aprobó el nuevo plan general

con vistas a quince años y posteriormente hace escasamente un año el plan especial san miguel anaka que prevé

son de protección oficial y todo eso se aprobó con el voto favorable del partido popular en el ayuntamiento de irun pues eso significa señor sémper aplastante nos dice que es incompatible la ampliación de la pista del aeropuerto de hondarribi con el mantenimiento del plan

por lo tanto en el ejercicio de ese liderazgo que usted reclama a los demás debería en primer lugar intentar dárselo a sí mismo y tendría que explicar a los irundarras y a todos los guipuzcoanos el partido popular por qué opta

llame al ayuntamiento por qué opta si opta por la ampliación de la pista de hondarribia o bien opta por todas las promociones de viviendas previstas en la zona de san miguel anaka que insisto son

novecientos son de protección oficial y tiene que hablar claro por eso yo digo que de una manera directa desde el ayuntamiento de hondarribia ustedes se oponen a la ampliación sí estaba hablando con el señor alonso no se ha dado cuenta que le pedí yo también un liderazgo

y por tanto ahí están en contra de la ampliación de una manera directa y de una manera indirecta mediante la aprobación el programa urbanístico de san miguel anaka están también en contra de la ampliación de la pista en la práctica por lo tanto

y que tendría que explicar a los irundarras y a los guipuzcoanos el partido popular exactamente qué es lo que propone si lo que propone es el desarrollo de toda esa zona urbanística la más importante probablemente de toda gipuzkoa

conjuntamente con la de txomin enea porque además quiero decir que nosotros también somos guipuzcoanos y yo soy guipuzcoano del goierri de beasain más en concreto

o bien opta por la ampliación de la pista del aeropuerto de hondarribia ejerza su liderazgo y sobre todo un poquito de claridad y coherencia

egun on denoi no se puede aburrir más o sea no se puede aburrir más

manido remanido conocido nadie nadie nadie sabe lo que se quiere hacer con este aeropuerto a día de hoy

y si esta frase tan tajante la digo yo es porque parece ser que en este hemiciclo no hay valentía política suficiente para decirlo a día de hoy nadie sabe lo que se quiere hacer con este aeropuerto y ahora nos sacamos la invención esa de la ampliación cuando ya había suficiente consenso y suficiente sentido común implementado en la sociedad guipuzcoana para no ampliar ese aeropuerto sencillamente porque los datos no dan no dan o sea

al estilo de no sé qué hacer con algo no funciona luego lo voy hacer más grande para que funcione ese es el estilo español lo voy hacer más grande todo a lo grande a lo grande a lo grande

la pasta pública ya está gastada esa es la solución al aeropuerto de hondarribia uno porque no se piensa como país efectivamente tu país y el mío no es el mismo o sea en mi país en euskal herria hay diferentes aeropuertos no hay tres de la comunidad autónoma vasca tenemos uno en biarritz que funciona excelentemente bien y hay uno ese es mi país y en mi país hay cinco aeropuertos para una población de tres millónes de habitantes yo creo que es más que suficiente lo que hay que decidir es cómo coordinamos esos aeropuertos porque también independientemente de que tu país sea distinto al mío también se tendrá que coordinar con el país vecino según tu concepción de país se tendrá que coordinar con biarritz

en cincuenta kilómetros de distancia se tendrán que coordinar el aeropuerto de hondarribia tiene afecciones evidentes una de ellas es que exactamente como tu país es como lo pintas tú

a partir de las diez creo que es porque afectan a espacio aéreo francés por tanto tenemos un problema de operatividad de vuelos tenemos un problema medioambiental yo tampoco soy técnico medioambiental pero hay un problema hay un lic ahí y si se hace una ampliación del aeropuerto

seria por tanto solo esa esa únicamente ya sería una razón suficiente para no

eso por un lado el tema de los vuelos y la operatividad pero es que además tal y como estoy diciendo el aeropuerto de bilbao funciona el aeropuerto de gasteiz necesita

y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un planteamiento serio el primer planteamiento es que se tiene que cumplir con el estatuto de autonomía ese que lleva cuarenta años sin cumplirse

cuando estáis vosotros en madrid y no habéis trasferido esta competencia entonces

esto no pinta nada esto no pinta nada por desgracia no pinta nada con respecto al aeropuerto de hondarribia por desgracia que el aeropuerto de hondarribia sea un aeropuerto fantasma donde hay un bar que abre una hora cuando vas

donde tenéis un director general que no le importa absolutamente nada de cómo está la pista de cómo están los servicios

porque si esa es la primera impresión que se lleva uno de euskal herria desde luego bastante lamentable es

está en manos del partido popular del gobierno español por tanto lo que no entiendo es a qué se viene aquí a pedir esto cuando esa competencia es exclusiva a día de hoy del estado español simplemente porque os da la gana

cuando la capacidad ejecutiva absoluta de licitar de diseñar

es exclusivamente vuestra además no solo del estado español sino vuestra en concreto no entiendo a qué viene yo no tengo tanto tiempo para perder

y que debatamos y que traigamos cosas aquí pero vamos a traer cosas un poco más serias

porque desde luego las instituciones guipuzcoanas no han tomado parte para nada en nada de lo que pasa en el aeropuerto de hondarribia

pero más allá de eso no hace nada no ha atendido las instituciones guipuzcoanas

tenemos una infraestructura que está aquí que debería ser gestionada desde aquí

ellos en madrid con un dinero de ellos o sea es que no entiendo la película no entiendo el punto no entiendo el planteamiento y por supuesto estoy totalmente en contra de la ampliación vamos a apoyar

la enmienda transaccional porque entendemos que en este tema hay que ser un poco más riguroso y un poco más serio

señora ugarte no hace falta que insista usted en que no he entendido nada de su intervención ha quedado

les lleva a estar en contra de todo de todo lo que suponga transporte movilidad y todo lo que suponga progreso de todas formas para usted y para alguno más que también ha hablado de competencia

que no hay debate sobre esto porque ni el propio gobierno vasco lo plantea en su informe de transferencias pendientes porque

uribe etxebarria cualquier modificación de la infraestructura se incardina directamente en el control del espacio aéreo

tal es así que ni el propio gobierno vasco solicita esa transferencia en su informe de transferencias anunciado y presentado hace relativamente poco esto es verdaderamente sorprendente

usted luego a la señora ugarte y a su compañero de formación

uribe etxebarria al que por cierto le animo también a una cosa que considero que además de la prudencia es importante cuando uno pretende dar lecciones venga con la lección aprendida efectivamente conozco bien en planeamiento de irun y conozco bien el desarrollo

y a quien le ha pasado el papel debería usted de darle un tirón de orejas porque una de las cuestiones fundamentales

por lo tanto residual pero usted debería de saber también que el planeamiento de irun

pregúnteselo a su concejal en irun que le ha pasado como le digo el papel con alguna que otra errata y ahí lo voy a dejar y al señor andueza le voy a recordar una cosa mire

oiga es que estamos en dos planos efectivamente yo creo que ustedes se han visto arrastrados por el partido nacionalista vasco en esa falta de interés por garantizar la viabilidad del aeropuerto porque no se puede entender que alguien que reniega de la conversión

de aval de la conversión señor andueza mire y esto no se trata de hablar de contradicciones pero

un poco de lo que hay que tener el señor arriola en el año dos mil nueve

consejero de infraestructuras de este gobierno hoy también consejero de otra cosa pero consejero también

era lo que usted es ahora secretario general del partido socialista en gipuzkoa al parecer defendía con más ímpetu los intereses guipuzcoanos decía el señor arriola la ampliación

razonable en relación con la ampliación de la pista del aeropuerto de san sebastián en hondarribia desde el punto de vista de los vecinos no les afecta más que la situación actual esto lo decía el señor arriola con quien usted tiene que aclararse las cosas es con su compañero de partido predecesor y miembro de este gobierno

su candidato a la diputación foral de gipuzkoa y firme defensor de la ampliación de la pista del aeropuerto de san sebastián al que le dieron un tirón de orejas socios de gobierno yo entiendo que usted no ha querido que se lo den a usted y por supuesto también con odón elorza aunque puedo entender que quizá eso le cueste un poco más pero es su diputado

y claro resulta si lo ha conseguido odón elorza lo va a conseguir usted y resulta señor

a lo que nos lleva a lo que nos lleva es a que efectivamente usted dice oiga primero veamos si el ranurado funciona y luego ya veremos si ampliamos la pista o qué hacemos

oiga exijamos pidamos al gobierno vasco liderazgo que el lehendakari o que la consejera

la voluntad de la diputación foral de gipuzkoa de los ayuntamientos de san sebastián de irun y de hondarribia oiga todos a una en defensa del territorio histórico y de infraestructuras por qué no

si ese aeropuerto estuviera en bilbao se hacía la ampliación sí o sí se hacía sí o sí

postergados siempre relegados y siempre problemas de todo orden y ustedes están subordinados a ese centralismo que ejerce el gobierno vasco

antes le he citado para bien porque ahí acertó pero tiene usted un problema con sus compañeros de partido en cualquier caso y lo digo sin ningún tipo de sorna lo de aceptar parabienes lo segundo tenía algo más de broma pues miren

yo creo honestamente que hoy ustedes perjudican con esta decisión la viabilidad futura del aeropuerto lo creo honestamente

no se despejan sino que todavía se ensombrecen más se oscurecen y yo les puedo asegurar que

al cierre del aeropuerto de san sebastían en hondarribia me opongo a esa agonía a la que ustedes le condenan me opongo a esa incertidumbre a la que ustedes

de gipuzkoa me opongo a poner en riesgo los puestos de trabajo

me opongo a que ustedes condenen a gipuzkoa a no ser moderna competitiva

pero también al conjunto del territorio histórico de gipuzkoa y lo que hoy van a votar es ponerle una puntilla o ayudar con una puntilla a que el aeropuerto y las infraestructuras sobre la que dependa mucha incertidumbre mal negocio para los guipuzcoanos cuando ustedes nos gobiernan mal negocio

que lo que hoy se va a aprobar despeja determinadas incertidumbres y al contrario va a servir para saber que estamos en contra

y por lo tanto obrar para que el aeropuerto sea viable sin tener que permitir esas afecciones negativas de las que he hablado antes y esto creo es importante porque creo que ningún grupo de la cámara ha dicho

que estemos por el cierre ni por dejar morir al aeropuerto todo lo contrario pero despejando esa incertidumbre con la que se lleva demasiados años

de la pista no que también ha condicionado ya el desarrollo urbanístico de irun aunque sí que es verdad que tengo que decir que a mí me hubiera gustado un poco más de claridad por parte del señor andueza

porque yo ya he dicho antes que me gustaría que quedase absolutamente claro

y han firmado una transacción que desde luego desde nuestro punto de vista lo deja claro pero luego aquí sale a decirnos

por lo tanto que ustedes sí le han concedido al señor sémper lo que ha pedido al menos en su discurso de dejar abierta determinada puerta mi grupo desde luego no quiere dejar abierta esa puerta nosotros nos oponemos radicalmente a la ampliación de la pista y no nos oponemos porque estemos en contra de esos tópicos del progreso ni mucho menos

está en un enclave muy especial en medio de un núcleo y está en un entorno especialmente protegido que si se amplían esas pistas

muy graves que no hay informes medioambientales que digan lo contrario

que sería muy muy complicado conseguir esos informes ambientales positivos por lo tanto en mi opinión no hay más debate nosotros dejamos nuestra posición clara es una absoluta falacia decir que la no ampliación de la pista del aeropuerto condena al aeropuerto

es una falacia y se va a demostrar con el tiempo se va a demostrar con el tiempo nadie en esta cámara

y desde luego yo irundarra no tengo ninguna especie de visión de ventaja sobre bizkaia sobre gipuzkoa ni mucho menos

queremos un aeropuerto viable y sabemos que si se hacen bien las cosas se puede hacer sin ampliar esas pistas por las afecciones que tiene por lo tanto nosotros votaremos en contra de su iniciativa

a que en el segundo turno sea rotundo en decir que el partido socialista está en contra de esa ampliación

porque además hemos visto que en el tiempo que llevamos que se están poniendo en marcha esas medidas de seguridad no ha descendido

en el mes de septiembre aumento un tres por ciento y en este último año en lo que va de año respecto al anterior ha aumentado en más de un cinco por ciento

a que fuese más rotundo en esto porque yo sí que creo

hay posiciones intermedias pero en sobre si la ampliación de la pista

negativas que hacen que no sea bueno ampliarla ahí sí que creo que hay que posicionarse sí o no a la ampliación de la pista y les pido

señor hernández no quisiera volver a parecer un prepotente pero qué quiere que le diga

a pedirme a que diga lo que usted quiere que diga y no lo voy a decir

que es que nuestra apuesta es por mantener la plena operatividad del aeropuerto bajo tres premisas la primera la seguridad de los viajeros y de los ciudadanos de las zonas colindantes segundo respetando

y tercero con el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales punto eso es lo que he dicho nosotros siempre vamos a apostar por la operatividad del aeropuerto

y entendemos también que puede ser complementario el tener tres

la optimización de nuestros recursos la compatibilidad de esos recursos y hacerlo verdaderamente competitivos yo creo que queda suficientemente claro

el señor sémper ha jugado al agravio y no a la responsabilidad

juegue a la responsabilidad a que haga política desde la responsabilidad y yo le he dicho y le reitero que prefiero ser prudente por qué porque hay unas obras es posible que den un resultado óptimo a tenor no de lo que digo yo que como le he dicho antes no tengo

sino de lo que dicen los técnicos del ministerio que ustedes gobiernan

óptimo para poder desarrollar esa infraestructura usted pide ambición

una cosa es ambición y otra cosa es egoísmo

es intentar plantear unas infraestructuras que de momento quizá no sean necesarias de momento

en cualquier caso usted decía que a este gobierno le falta liderazgo porque no ha pedido dentro de las transferencias pendientes en ese informe que hay la transferencia de la competencia mire sabe por qué no está se lo voy a decir yo por que luego viene usted aquí a decirle al señor uribe etxebarria que tiene que venir con la lección aprendida mire

no es una transferencia perdón es una encomiendo de gestión y por tanto no tiene por qué estar

y sin embargo está en el acuerdo de gobierno porque tanto estos señores como nosotros somos partidarios de que el gobierno nos haga esa encomienda de gestión

léase los papeles léase los papeles que está en el acuerdo de gobierno que lo vamos a solicitar

en fin en cualquier caso yo ya le digo y le reitero

prefiero ser prudente y prefiero esperar a esos resultados como ha hecho su ministro

y le reitero que el posicionamiento del partido socialista de gipuzkoa y por ende el del partido socialista de euskadi es el que yo le estoy exponiendo

yo que usted me preocuparía que sea precisamente usted quien coincida con los posicionamientos del señor elorza qué quiere que le diga

a mí me ha dado la sensación de que hoy usted aquí ha venido a echar una de postureo me parece muy bien legítimo pero que no cuela

y no se puede venir aquí a hacer política ficción y usted a lo que ha venido hoy aquí es a hacer política ficción a construir castillos en el aire

pueda ser materializable a tenor de las directrices europeas que tenemos encima de la mesa

le pediría un poquito más de prudencia y tal y como nos recomienda a los demás que atienda con más atención
a lo que dicen sus compañero en responsabilidades de gobierno muchas gracias eskerrik asko andueza jauna

si tiene a bien escucharme no sí

usted sí es capaz de hacer cuatro o cinco cosas a la vez

usted no solo no lidera no lidera el partido popular de gipuzkoa sino que

ha dejado bien claro tampoco es capaz de leer los informes ni tampoco es capaz de conseguir la información correcta y adecuada

de una posible ampliación de la pista

porque tiene una afección tiene una afección y tiene una afección absolutamente clara señora bengoechea no se me sulfure tranquila

lasai ez kezkatu tiene una afección y tiene una afección clara por lo que son las reglas lógicas de seguridad

viajeros como sobre todo en este caso de vecinos al margen de o añadiendo otro tipo de normativas sobre ruido etcétera etcétera etcétera

no podría llevarse a cabo tal y como ha sido aprobada en caso de que se procediera a la ampliación de la pista aparte de que ya los trabajos de la promoción urbanística están ya bastante adelantados se están negociando los convenios con los propietarios y antes de final de año las excavadoras van a entrar

y una cosa como la que usted propone lo único que aportaría es incertidumbre y poner en grave riesgo esa promoción

al agravio comparativo y al lloriqueo

unas responsabilidades en relación a aena unas responsabilidades en relación a la transferencia de la competencia exclusiva que está prevista en el propio

en definitiva al agravio para esconder sus debilidades y su falta de responsabilidad mire yo soy guipuzcoano la consejera también

y yo no voy a poner en cuestión que usted no sea guipuzcoano usted es guipuzcoano pero lo que sí me queda claro es que

tienen un solo juntero en juntas generales de gipuzkoa entonces yo no voy a poner en duda su condición de guipuzcoano pero lo que sí tengo claro es que políticamente

no les quieren y a partir de ahí quizá tendría que sacar algún tipo de conclusión nosotros seguimos teniendo un compromiso claro y firme por la infraestructura del aeropuerto de hondarribia donostia san sebastián teniendo en cuenta

que influyen en esa infraestructura que es como es apostamos evidentemente por el desarrollo económico y social del territorio guipuzcoano

toda euskadi y ahí lo demostramos yo creo que día a día eskerrik asko

asko disfrutatu dudala hainbeste gauza entzuten señor presidente de los socialistas guipuzcoanos

ah secretario general vale guay hay que ser prudente hay que ser prudente pues la prudencia indica que los aeropuertos hay que transferirlos hay que transferir las competencias la encomienda de gestión es otra cosa

te toca hacer algo y tienes una competencia y temporalmente para algo concreto le encomiendas a otra institución o empresa pública que haga la gestión temporal eso es una encomienda de gestión en este caso con los aeropuertos

la transferencia de la competencia que está recogida en el estatuto de autonomía y que está sí está recogido y está en el informe de transferencias que lo acabo de repasar y lo tengo

pero los aeropuertos sí deberían ser competencia de la comunidad autónoma o sea y en eso creo que todos deberíamos estar ya conformes

pero antes que guipuzcoana soy vasca igual por eso de que estoy en la muga entre araba

y por tanto no sé lo que me pasa pero pienso como vasca y como vasca pienso que el aeropuerto de hondarribia jamás se debió hacer allí

no sé qué ingeniero tuvo la iluminación de hacerlo allí pero jamás se tuvo que hacer allí y de aquella iluminación

es un tema que nos preocupa y nos viene ocupando desde el inicio de la legislatura hasta ahora hemos impulsado iniciativas sobre políticas de refugio sobre acogimiento derechos de personas refugiadas sobre política fronterizas y su impacto sobre las personas que están de paso en su camino hacia una vida digna

hemos propuesto comparecencias y también queremos hablar sobre la opinión del gobierno vasco en relación a la construcción de un muro de la vergüenza en euskadi beraz

eta gizarte kohesiorako politikak sendotu eta bultzatu nahi ditu y estamos satisfechas y reconocemos y agradecemos el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios

pero voy a pasar a hablar de la iniciativa decíamos en la justificación que la estrategia vasca por la inmigración finalizó su vigencia a finales del año dos mil dieciséis como compromiso ciento cuarenta del programa de este gobierno aparece actualizar la estrategia vasca por la inmigración con horizonte

más o menos reconocerlo nos encontramos en un tiempo en el que cada vez con mayor frecuencia hay situaciones que pueden poner en riesgo la convivencia

solamente un seis coma cinco de la población residente la simpatía hacia la población migrada se da en positivo en euskadi hacia quienes proceden de culturas que se asemejan a la nuestra como la unión europea o argentina en el caso de américa por el contrario

la valoración de estas tres nacionalidades empeora año a año y eso es algo de lo que todas debemos preocuparnos y ocuparnos porque son en los casos de marruecos y rumanía las que están entre los tres primeros colectivos migrados

el cincuenta y uno coma seis por ciento de la sociedad vasca sigue teniendo la percepción falsa de que las personas migrantes se aprovechan de la renta de garantía de ingresos sabemos que esto no se ajusta

como tampoco se ajusta el que un cuarenta y tres coma dos por ciento piense que la presencia de personas extranjeras per se aumenta el machismo como tampoco

que despierta desconfianza en la ciudadanía suponemos que la cobertura mediática demasiadas veces plagada de estereotipos y de desinformación

no contribuyen en absoluto a que la sociedad de acogida mire con confianza a personas que practican la religión musulmana pero la administración pública en su rol de liderazgo sobre las políticas de integración y de convivencia ha de contemplar esto

que colaboren en la construcción de una ciudadanía más cohesionada que garantice

tenemos datos suficientes para afirmar que además de lo que ya se hace y desde luego en nuestra opinión habría sido imprescindible que la estrategia vasca para la inmigración la ciudadanía y la convivencia intercultural se pudiera en marcha este mismo año y que nunca

más aun cuando en agosto supimos a través de la prensa y es una pena que ni la consejera ni el lehendakari estén aquí hoy que coincidiendo con el atentado de barcelona se está convocando un grupo de trabajo integrado por tres departamentos para abordar el tema del yihadismo y que se presentará a finales

integral y hacer un planteamiento cito textual de cara a la integración de los colectivos migrantes que puedan ofrecer algún tipo de deriva hacia dinámicas terroristas en este contexto entendemos que el gobierno vasco y más en concreto el departamento de empleo y políticas sociales está trabajando en la nueva estrategia de migración

un plan de convivencia y derechos humanos son tres espacios sin una estrategia clara que agrupe y ordene

que esperamos que no sucedan esperamos que no se superpongan planes porque eso además iría en contra de la articulación intra e interinstitucional que la estrategia vigente pretendía

y un enfoque contra algo con un marcado perfil de seguridad y en este caso contra el yihadismo

participar esperamos también que en la propia estrategia

o no ocupe más espacio un enfoque contra el yihadismo sobre el de derechos humanos un enfoque integral un enfoque de ciudadanía y un enfoque de convivencia

por esto y para construir en este sentido en esta iniciativa y en este acuerdo de hoy pretendemos dar un impulso a la tan necesaria estrategia vasca de inmigración ciudadanía y convivencia así que presentamos un acuerdo por unanimidad que inste al gobierno a presentar antes de finalizar el año dos mil diecisiete la última evaluación de la estrategia vasca por la inmigración

no se ha presentado y además se insta al gobierno para que en los seis primeros meses del año dos mil dieciocho aunque ya vamos con retraso

dos mil veinte tal y como se avanzó en la reunión del foro para la integración y participación social el pasado seis de septiembre durante el proceso de elaboración

también se deberá contar con la participación de los agentes previstos en el foro para la integración y participación social de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes donde se integran diversos agentes institucionales sociales y sindicales entre otros representantes del ikuspegi observatorio vasco de la inmigración miembros de biltzen

y convivencia intercultural y el ararteko de cara a garantizar un marco de consenso

como este acuerdo de hoy sea compartida e implique a la ciudadanía como garantía de un desarrollo integral de políticas defensoras de los derechos humanos y de la convivencia y por último acordamos que es fundamental fortalecer la estructuración y la articulación de consensos interinstitucionales así como la participación

de la sociedad civil implicados en la temática desde elkarrekin podemos además de esperar para poder aportar a ese plan esperamos que esta estrategia defina y aporte recursos

desde una óptica global y con el objetivo de defender los derechos maximizar la eficiencia del trabajo

para decir que cuando recibimos la propuesta del grupo elkarrekin podemos desde luego era imposible negarse a ella porque era

y era un asunto que incluso estaba recogido en el programa de gobierno de esta once legislatura sin embargo nosotros

en aquel momento quisimos también y agradezco a la señora guanche que fue receptiva quisimos hacer una aportación constructiva por una razón en aquella primera versión se daba un plazo de seis meses

entender un poco más que cómo funcionamos y cómo seis meses podía quedarse corto y por eso ahora

que es una cosa por supuesto supernecesaria y luego seis meses para realizar el plan yo creo que nosotros en esos plazos sí que vemos que se puede hacer y por eso agradecemos la receptividad de la señora guanche pero acordado esto igual

de esta iniciativa miren yo coincido también y no lo habíamos hablado con algo este tiene que ser un plan transversal

hay distintas iniciativas que de una manera u otra al mismo fenómeno y se dispersarían fuerzas si no lo convertimos en un plan transversal

referirnos a cómo estamos organizados aquí afecta incluso a varias consejerías afecta a la consejería de sanidad desde luego

grupos de personas que vengan con dolencias con enfermedades y que tendrán que ser atendidas afecta a juventud por ejemplo porque tenemos un gran número de personas jóvenes afecta a educación

con la educación permanente de adultos porque ha hecho una labor fantástica a lo largo de los años en ayudar a estas personas

afecta incluso a seguridad porque es que ayer mismo en la comisión de derechos humanos vino una persona de sin fronteras o quitando fronteras luego lo dice usted señora guanche no me recuerdo ahora el nombre

nos explicó algunas cosas yo sin estar totalmente de acuerdo con sus puntos de vista los hechos son tercos y por ejemplo

que por bilbao en estos momentos están pasando sobre todo mujeres que las mafias llevan a la prostitución

por bilbao y muchas de ellas son menores nos habló y es una persona que tiene datos de niñas de diez y doce años

en los que dicen que son mayores de edad diez y doce años

es una ong exactamente es una organización que

nombres y apellidos a las personas en centrarse en los individuos por tanto cuando ellos dicen el caso de estas niñas los pueden documentar y eso está pasando en estos momentos por bilbao

por tanto también afecta a la consejería de seguridad se necesitaría un plan específico

no contra la trata cuya explotación tiene lugar aquí pero contra euskadi como vía de camino de la trata

en fin por eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho la señora guanche antes que ya les digo que no lo habíamos hablado que esto tiene que ser una perspectiva

multilateral y tiene que ver una transversalidad en este plan de inmigración eso es lo que esperamos

el proyecto del gobierno vasco cómo quiere liderar este tema a qué me refiero en esto me refiero a que siempre hablamos de la participación de múltiples

pero la responsabilidad no podemos olvidar que

es nuestra el gobierno tiene que ejercer ese liderazgo y tiene que ejercer esa competencia

pero como les dije el otro día ni el gobierno ni el parlamento ni las instituciones somos animadores socioculturales no somos personas que queremos liderar proyectos entonces nos gustaría saber

con qué liderazgo aborda el gobierno vasco esta cuestión

enriquecerla con los aportes de las asociaciones de la sociedad civil

no olvidemos que esas asociaciones súper legítimamente

la sal de la tierra trabajadores infatigables están defendiendo intereses

se le puede decir que defiende un interés particular pero sí intereses con un punto de mira más estrecho más sectorial

el gobierno vasco es el que tiene que poner la panorámica del interés general en un plan de inmigración eso es lo que esperamos nosotros

pues por lo menos felicitarnos a todos porque hemos conseguido este primer consenso

muchas gracias señora presidenta empezaré pues diciendo que era helena maleno garzón la que compareció

ayer portavoz de caminando sin fronteras un colectivo íntimamente ligado a la defensa de los asuntos que hoy nos traen entonces me parecía de recibo empezar por mencionar su nombre y porque

alguna denuncia en su condición de mujer entonces vaya en ese sentido el reconocimiento porque de verdad es una persona que está muy íntimamente ligada

efectivamente hemos hecho yo creo que un buen acuerdo entre todas y además entre todas lo voy a repetir porque

del asunto hemos hecho un buen acuerdo pero yo creo además que

en ese punto que refiere del acuerdo de gobierno yo creo que precisamente todas las actuaciones que ha mencionado la proponente y es la que ha permitido que esto se debata aquí y por lo tanto lo agradezco se refiere a un punto pero es cierto también que el acuerdo de gobierno basa todos sus principios y compromisos en una actuación muy global y ahora no me ha dado tiempo

me consta que establece la universalidad en la salud me consta que en el pacto educativo apuesta por esa integración que defiende la señora guanche que también ha venido a defender

habla también del equilibrio social de la interculturalidad y la convivencia en los centros

incluso avanzar en una integración equilibrada de los estudiantes inmigrantes en la red pública y la privada que todavía en esa cuestión nos queda mucho por hacer habla también de la cultura plural de la sociedad vasca habla también del compromiso con la agenda dos mil treinta del pacto social por la inmigración también y por fin es verdad es una de las bases fundamentales de convivencia y derechos humanos por lo tanto yo creo que con el acuerdo político tan amplio que existe en esta cámara

de manera integral transversal porque no cabe otra forma de abordar una estrategia de inmigración como nos pide la sociedad vasca que es mayoritariamente positiva en favor de lo que hoy defendemos

tenemos la implicación y el compromiso suficiente del gobierno y ahora nos tocará a los y las parlamentarias sostenerlo con estos debates que efectivamente con independencia de a quién afecte porque

de euskadi y también de las fronteras nos toca defender por lo tanto en ese sentido yo espero y deseo que esa transversalidad que puso en marcha el tercero plan en concreto luego vino la estrategia última pero el tercero plan aprobado con el gobierno de patxi lópez

interdepartamental y además colaboración con las organizaciones sociales porque ese foro está precisamente porque lo aprobó ese tercero plan aprobado en ese momento yo creo que era en el dos mil trece era dos mil trece dos mil quince no lo recuerdo ahora bien pero por eso

a todas las que estamos ocupadas y preocupadas porque me parece muy importante lo que ha señalado

todas las personas o las pocas personas que ahora nos escuchan para poder trabajar efectivamente porque esto como decía la señora kortajarena nos ocupa y nos preocupa

conocemos perfectamente que somos interdependientes y por tanto globalmente responsables del problema que tenemos en la integración

a compartir no a llevarse muchas cosas con la sociedad vasca las políticas de inmigración por tanto sus planes sus actuaciones y sus

la oportunidad de poner en marcha esas políticas innovadoras lo he dicho nos apoya la mayoría de la sociedad vasca y los acuerdos sólidos que se han llegado

en esta materia como conocen todas aquellas personas a las que me dirijo por tanto nos queda hacer esa política

para la movilidad humana el mundo global para los bienes y capitales para la información y los mercados no puede ser un mundo cerrado para la movilidad de las personas tenemos que afrontar los retos de grandes masas de población moviéndose por el mundo y tenemos que garantizar

pero también del hambre y de la explotación esos también en ese sentido quiero decir que no podemos dejar de lado

y eso deberá formar parte de la estrategia vasca del dos mil veinte porque a nada que nos descuidemos rebrotan y resurgen cada vez

por lo tanto para nosotros para nosotras las socialistas entendemos que no hay otra alternativa que combatirla somos conscientes

pero a las personas que tenemos principios e ideario no nos queda otra que seguir combatiéndolo porque a nada que bajemos la guardia volverán a utilizarlo contra las personas armas tienen para defenderse termino porque no creo que vaya a aportar nada más de todas aquellas personas que me han precedido euskadi es afortunadamente un país plural en lo social en lo cultural

y este parlamento este gobierno sus leyes sus planes sus estrategias y sus actuaciones están obligados a ser el máximo reflejo de esa diversidad no creemos muros ni levantemos muros ahora mismo solo existe coincidencia acuerdo consenso y defensa de todos aquellos todas aquellas que lo necesitan más que nosotros muchas gracias

para lograr una sociedad cohesionada y marca como debe ser el camino al que se dirige la acción de gobierno además de servir de guía para orientar las decisiones estratégicas

y las diferentes culturas la integración de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes en euskadi resulta fundamental en una sociedad moderna como es la nuestra

que conocen de primera mano la situación una colaboración esencial

las medidas que se vayan a tomar de la forma más plural y concreta posibles sus objetivos están muy definidos y son la estructuración y articulación intra

el acceso al empleo o la formación y al éxito escolar como vías para la integración el acceso a la ciudadanía plena y movilización de los recursos el acceso y la gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos la participación

y la xenofobia la actualización de esta estrategia con horizonte dos mil veinte que nos trae hoy aquí es necesaria está prevista y se va a cumplir como se ha hecho con las anteriores de hecho

dentro de los compromisos y además está realizando también la evolución

empleo y políticas sociales siempre ha estado y seguirá estando como lo está también la integración

en euskadi la discriminación por razones de origen y el cumplimiento de los derechos humanos no hay duda de ese compromiso que mantiene el gobierno vasco ni del trabajo que se está realizando para actualizarla además

la última vez concretamente fue el pasado seis de septiembre cuando explicó en la reunión del foro para la integración y participación social de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes en el país vasco

conoceremos el resultado foro que por cierto fue creado en dos mil dos y resulta fundamental en el desarrollo de la estrategia y que me gustaría poner en valor porque es el cauce natural para desarrollarla porque abarca a todos los agentes implicados treinta y siete en total entre ellos los miembros de las administraciones públicas

es un órgano consultivo y permanente que sirve para reflexionar y coordinar el trabajo de todos esos agentes que lo componen a través de sus comisiones realiza un trabajo conjunto

del colectivo inmigrante y aportando conclusiones enriquecedoras que después

así una estrategia compartida y abierta las vascas y los vascos sabemos que la inmigración es positiva y necesaria y que enriquece nuestra cultura y nuestra sociedad euskadi es un país abierto y acogedor una ciudadanía inclusiva y tolerante con personas de distintos orígenes algunos de ellos hace mucho que vinieron y otros acaban de hacerlo pero todas quieren incorporarse con normalidad

actualización hemos firmado una enmienda transaccional entre todos los grupos que sin duda compartimos todas

presentar esa evaluación antes de que finalice el año el segundo

de esa nueva estrategia que insisto que ya se está llevando a cabo y sí que es cierto que aquí el tiempo es un poco escaso porque si queremos que la estrategia sea lo más participativa posible y cuente con el mayor consenso posible pues nos va a llevar un poco de tiempo reunirse con todos los agentes implicados y contrastar sus opiniones

y luego tercero contar durante todo el proceso de elaboración con la participación del foro de la integración

como ya he mencionado antes la estrategia se conjuga con el foro y con los representantes de los agentes que lo componen

de gobierno vasco pero cuanto más participativo y abierto sea pues mejor cuarto fortalecer la estructuración y articulación de consensos interinstitucionales y continuar profundizando con los agentes implicados lo mismo consideramos que cuanto mayor sea

pues más positivo va a resultar para todos y mejor se va a hacer ese trabajo y quinto evidentemente que una vez

y para finalizar bueno pues felicitarnos a todas por el consenso al que hemos llegado porque yo creo que resulta positivo eskerrik asko

bertatik bai zure baimenarekin eserlekutik señora bengoechea solo una

como ya ha dicho la representante del partido socialista era helena maleno quien nos acompañaba ayer en la comisión y nos habló

nos habló de cómo la securitización de las políticas migratorias impide el ejercicio de los derechos

y sobre todo que es con lo que yo me quedo hoy aquí que entiendo que vertebra este acuerdo de la necesidad de realizar políticas

con eso me quedo me quedo también con su acuerdo y con el de todos los grupos y desde luego con la intención de continuar vigilantes a que estos acuerdos se conviertan en realidad eskerrik asko

bertatik eskerrik asko desde el escaño no pensaba intervenir

de este acuerdo hoy porque me temo que luego en el desarrollo del plan

a la representante del pnv sobre todo por algunas cosas que le he oído pero vamos alegrémonos por hoy mañana

hombre yo creo que lo mejor es mantener esa disposición para el acuerdo de hecho

pasando por la sociedad vasca esté posible esté presente en la elaboración de esa estrategia y no entendería nadie al menos la sociedad vasca que todos los partidos no hiciéramos posible ese acuerdo también en la estrategia yo lo confío si no hace falta nadie no hay exclusiones

habernos costado tanto realizarlo y en eso estamos eskerrik asko

señora bengoechea que no sea usted tan negativa simplemente

gracias señora presidenta señorías presento esta iniciativa en nombre del grupo popular que hace referencia a un mandato de la ley cuatro barra dos mil quince de veinticinco de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo que prevé la aprobación por parte del gobierno de una

y restauración de las funciones naturales y de uso de los suelos de la comunidad autónoma vasca la planificación en el país vasco

en dos planes y una ley una ley que se hizo en el dos mil cinco

en el dos mil quince pero planes lo que son herramientas de acciones tenemos dos uno del mil novecientos noventa y cuatro un plan director para la protección del suelo que no llegó a aprobarse pero sí se fue aplicando las medidas que en él se contenía hasta el dos mil cinco cuando se aprueba la ley

ley de la que se deriva el plan de suelos contaminados del país vasco dos mil siete dos mil doce

que estaba alineado con la estrategia ambiental vasca dos mil dos dos mil veinte y que es el que está vigente en este momento porque es la única herramienta que tenemos de acción en este momento

incorporar una disposición transitoria que insta al gobierno a elaborar el plan de suelos contaminados y le dice además

de la ley se aprobará una estrategia para la protección conservación y restauración de las funciones naturales y de uso de los suelos el plan de suelos contaminados

para esta legislatura pero esta estrategia no figuraba en esa planificación por lo que nuestro grupo pareciéndonos que es una herramienta muy interesante

nos parece que debe empezar a trabajar esta estrategia y es por lo que hemos presentado esta iniciativa como les decía en el plazo de dos años

que contemple la protección conservación y restauración de las funciones naturales y de uso de los suelos que puedan degradarse como consecuencia

la pérdida de biodiversidad el sellado los deslizamientos de tierra y las inundaciones estas son las principales amenazas para los suelos en europa y también en españa y en nuestra comunidad autónoma

en el que tanto la agencia europea de medio ambiente como el centro común de investigación de la comisión europea

y han demostrado que las políticas llevadas a cabo hasta ahora a nivel europeo

han sido insuficientes para proteger enteramente los suelos y por tanto insisten en que es necesario insistir en las medidas que se deben de aplicar para proteger los suelos y conseguir

neta cero del suelo tal y como se recoge en los objetivos

y esta protección debe pasar por algunos aspectos que son básicos como es salvaguardar el suministro de alimentos de calidad tanto hoy como en el futuro contribuir

contribuir a la gestión y mitigación de los efectos de las inundaciones los fuegos hemos visto

y con algunas catástrofes naturales por lo tanto hay que insistir en las medidas para proteger los suelos

también proteger la biodiversidad y sus componentes conservar las áreas recreativas sanas mantener la geodiversidad y el patrimonio cultural y arqueológico

el suelo los suelos son fundamentales para nuestra vida y necesitan protección no dañarles y si se dañan

inmediata para repararlos porque el suelo es un recurso no renovable un recurso esencial para el medioambiente sostenible y para el que hay que diseñar medidas y políticas para su protección para el grupo popular desde luego

un conjunto de medidas y una herramienta de trabajo que nos parece que esta estrategia así lo debe de señalar que

debe formar parte de esta estrategia y creemos que es un trabajo importante a desarrollar

esta estrategia desde luego debe contar con recursos humanos y económicos necesarios

y también de los distintos departamentos del gobierno porque es una estrategia

y que debe contar con esa colaboración porque solo desde la implicación tanto de las administraciones como de los distintos departamentos podremos conseguir una

nosotros en la iniciativa planteamos el plazo de un año el gobierno nos ha pedido algo más de plazo hemos puesto finales de año y hemos incorporado lo que les decía antes

colaboración de los departamentos del gobierno vasco afectados y los medios humanos y materiales necesarios para que se elabore para finales del año dos mil dieciocho una estrategia

de las funciones naturales y de uso de los suelos que puedan degradarse como consecuencia de la erosión de la pérdida de materia orgánica la salinización la compactación la pérdida de biodiversidad

los deslizamientos de tierra y las inundaciones entre otros aspectos que pueden dañar el suelo nos parece que es una herramienta de obligado

y porque nos parece que requiere de un trabajo importante y sería bueno que

más adaptada a la realidad que el plan que tenemos que es del dos mil doce esperemos que también el plan de suelos como dice el gobierno lo elabore cuanto antes muchas gracias al grupo enmendante por la disponibilidad para llegar a esta enmienda de transacción

por lo tanto agradecer la colaboración de todos

el suelo es un recurso no renovable es decir es un recurso natural limitado que tiene un ritmo de regeneración muy inferior a las tasas de extracción o explotación de sus bienes y servicios ecosistémicos por lo que para mantener su sostenibilidad en el tiempo es necesario realizar una gestión sostenible del suelo

marco legal y administrativo para la protección del suelo ha estado muy focalizado en el problema de la contaminación química

que pueden tener una incidencia importante en aquel especialmente la agricultura el desarrollo regional

y la investigación es por lo que consideramos muy importante desarrollar la estrategia para la protección de suelos en la comunidad autónoma vasca pero hay que destacar que no se deriva únicamente del mandato legal

cuatro barra dos mil quince de veinticinco de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo del país vasco

e insustituible y que debe de incorporar a un elenco de organismos e instituciones responsables de las políticas sectoriales y su aplicación tanto desde lo público como desde lo privado esta estrategia deberá responder sin duda los principios de la citada carta mundial de los suelos revisada en el año dos mil quince

la unión europea aprueba su estrategia dos mil veinte una estrategia para un crecimiento inteligente sostenible e integrador que en dos mil once materializaba en una hoja de ruta hacia una europa eficiente en el uso de los recursos y que se encamina

hacia la degradación neta cero del suelo en esta hoja de ruta en relación a la protección del suelo se enmarcan los siguientes objetivos para la ocupación y sellado del suelo se establece

las políticas de la unión europea tomarán en consideración su impacto directo e indirecto sobre el uso de la tierra en la unión y en el mundo y el índice de ocupación de suelo encaminado hacia el objetivo de una ocupación cero de suelo en dos mil cincuenta la erosión de suelos se habrá reducido y habrá aumentado su contenido en materia orgánica

por buen camino en este escenario es donde ha de desarrollarse la estrategia para la protección de suelo de euskadi elaborada por el departamento de medioambiente política territorial

en la materia esta estrategia debe suponer un salto cualitativo en la protección del suelo como recurso deberá estar alineada con las directrices y la hoja de ruta europea y con una concepción integral de sus funciones que necesariamente exigirá de la buena colaboración de las administraciones involucradas y la coordinación

protección de los recursos hídricos etcétera la dificultad y la gran virtud de

precisamente su transversalidad y su éxito deberá venir de la coordinación y colaboración de los organismos públicos competentes pero también de la participación de otros agentes públicos y privados como universidades centros tecnológicos entidades acreditadas en el ámbito de la protección del suelo asociaciones empresariales etcétera

hace instar al gobierno vasco tal y como hemos hecho en la transacción que hemos firmado a cometer la realización de la estrategia en el plazo más breve posible y a eso

aurrean la degradación del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual y también futura del mismo para seguir desempeñando sus funciones y

una causante importantísima de la degradación y de la contaminación de los suelos y también hay que poner en valor y así se hizo también en el pleno que he mencionado que en euskadi hemos sido pioneros en la aprobación de normativas que van dirigidas a prevenir y corregir

más o menos pedagógica de la postura que vamos a defender fundamentalmente porque creemos que en esta cuestión del suelo hay un enorme desconocimiento si yo les preguntase ahora cómo se forma el suelo o cuál es su composición seguramente

no podrían responder y si les digo que formar un centímetro de suelo lleva mil años de evolución seguramente se quedarían sorprendidos pero la realidad es esa el suelo como se ha dicho es un recurso prácticamente no renovable que tenemos que proteger sí o sí los seres humanos conocemos cuáles son las funciones antrópicas del suelo lo utilizamos para soportar las infraestructuras en las que vivimos y nos desplazamos lo utilizamos para extraer materiales de construcción

para conocer cuál fue nuestro pasado a través de la búsqueda de vestigios culturales y arqueológicos pero tenemos un enorme desconocimiento de cuáles son las funciones naturales del suelo apenas sabemos y antes lo ha mencionado la señora lópez de ocariz que el suelo es como una enorme esponja que retiene el agua y evita riadas e inundaciones pero a la vez

y llevarla a los acuíferos el suelo regula el clima suaviza los cambios de temperatura y retiene el carbono que han fijado las plantas el suelo nos provee de alimentos pero también nos provee de energía a través de la biomasa y la leña y el suelo es el hábitat de multitud de seres vivos agua limpia alimentos energía clima estable deberíamos de concluir que sin unos suelos sanos la supervivencia del ser humano está comprometida está realmente comprometida pues la respuesta es que sí ahora mismo

o fuertemente degradados y en áfrica ese porcentaje asciende al cuarenta por ciento no es de extrañar

alimentos y energía sea áfrica precisamente el continente que ahora mismo está

mayores índices de hambruna de pobreza de inmigración etcétera las causas de la pérdida de suelo fértil

lluvias e incendios y les puedo asegurar que el cambio climático no va a mejorar esto también hay causas provocadas por el ser humano entre ellas la agricultura intensiva la agricultura industrial la agricultura industrial provoca que se agoten los nutrientes del suelo y la materia orgánica que contiene

y por lo tanto pierde sus cualidades les voy a poner un ejemplo en el estado español es la franja mediterránea mayores índices de erosión sufre en los años setenta la mayor parte de las frutas y hortalizas se producían en lo que se llamaba la huerta valenciana

en los noventa utilizábamos los invernaderos almerienses

en marruecos en los años dos mil diez aunque les parezca mentira ya se están cultivando en el sahara todavía más abajo utilizando las aguas relipticas que el sahara alberga desde hace cinco mil años y esto es insostenible

en euskadi también tenemos problemas tenemos problemas de erosión fundamentalmente provocados

por la mala gestión que se está haciendo de nuestro montes estamos llenando nuestros montes de pinos y eucaliptos que acidifican el suelo y lo hacen inviables para cualquier otra función productiva y

son causantes de erosión directa y me estoy refiriendo

y no estamos haciendo nada en este sentido pero sí podríamos hacer podríamos hacer mucho más podríamos gestionar nuestros montes de manera que

de valor maderero añadido más alto eso provocaría una disminución de la erosión del suelo y al mismo tiempo nos permitiría tener un sector maderero mucho más prospero y con un mayor valor añadido y nuestros cultivos podrían empezar a utilizar técnicas de agroecología que son a día de hoy el futuro los fertilizantes químicos son el pasado la agroecología es el futuro

y para tener una estrategia necesitaríamos tres pilares fundamentales en primer lugar tener recursos humanos y materiales y a día de hoy la viceconsejería de medio ambiente no los tiene

hace dos semanas en esta misma cámara en segundo lugar se necesitaría impulso político que tampoco lo hay y por eso es de agradecer especialmente la iniciativa del grupo popular para traer este tema aquí tan desconocido y por lo tanto que tan poco importancia le damos a pesar de la relevancia que tiene para la vida humana

en el tema de los suelos degradados tienen papel que jugar

el departamento de ordenación del territorio para cambiar las directrices de ordenación territorial y preservar los suelos agrícolas naturales que todavía tenemos que no son tantos tendría un papel sprilur por la recuperación

agrícolas que está haciendo ahora mismo y tendrían un papel las diputaciones por todas las competencias que tienen en materia de agricultura

ni tenemos impulso político ni existe la colaboración institucional por eso agradecemos al grupo popular su iniciativa y anunciamos que vamos a dar un apoyo crítico

es un mayor impulso para proteger el suelo para conservar el suelo y para poder legarlo a las siguientes generaciones de la mejor manera posible muchas gracias

empiezo citando a rubén blades la canción de pedro navaja la vida te da sorpresas

quién me iba a decir a mí que con la que está cayendo hoy que creo que es el día ciento cincuenta y cinco de octubre

a dos miembros del partido popular ante lo he hecho con el señor barrio por esa capacidad de hablar sin preparar un tema

con una evidente ironía pero en este caso quiero felicitar muy sinceramente a

por meter introducir esta iniciativa que presione al gobierno para que ejecute las propuestas

que se prevé la aprobación por parte del gobierno de una estrategia para la protección conservación y restauración de las funciones naturales y de uso de los suelos que puedan degradarse como consecuencia de la erosión la pérdida de materia orgánica la salinización

lo que hoy ha calcado el partido popular para traerlo como iniciativa de lo cual nos alegramos mucho artikulatuari egindako proposamenean

orain arte gertatu den bezala en resumen y termino nos alegramos mucho de que el partido popular

y nos alegramos también de que utilice el pleno para sacar adelante nuestras propuestas así que obviamente votaremos a favor de hecho

con lo que no pensamos cobrar el copyright aunque eso sí

de grupos que si hubieran salido adelante nuestras propuestas en el articulado las que propusimos originalmente hubiéramos ganado un par de años preciosos en el cuidado y la recuperación de nuestro suelo

de una estrategia tal y como pedimos ya en el año dos mil quince llegará dentro de un año y pico dentro de un año con algún año de retraso insisto pero en cualquier caso

gracias señora presidenta desde el escaño para agradecer el apoyo que va a tener esta iniciativa y yo señor otero ha tenido casi un año para presentar una iniciativa y

lo bueno es que se consiga que se acelere esta iniciativa y que además se dote de los recursos económicos y humanos necesarios porque es verdad y lo ha dicho el señor portavoz

diciendo que efectivamente hay pocos recursos humanos y también se puso de manifiesto por la viceconsejera en comisión y por lo tanto lo que hemos hecho es incorporar

ese punto a la iniciativa usted sabrá que se iniciaron los trabajos de esta estrategia en la legislatura anterior

en enero de dos mil dieciséis por lo tanto iniciarse se iniciaron pero por algún motivo se quedaron parados por lo tanto lo que hemos hecho es retomar esa iniciativa

finos en el seguimiento de estas cuestiones porque creo que nos estamos jugando cuestiones muy elementales para el futuro y para la sostenibilidad de todos y de todas por tanto yo apelo

parlamento podamos hacer al trabajo que desde el departamento de medio ambiente se pueda hacer para hacerlo posible pues no será fácil pero desde luego yo creo que voluntad existe hay gente que piensa que

imposible pues bueno hoy hemos conseguido lo imposible que el señor
otero y la señora lópez de ocariz se pongan de acuerdo por tanto eso también desde luego es un motivo de alegría eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak